ekarri du pentsioetan murrizketa berri bat ha bajado la pensión inicial porque se han incrementado el número de años que se utilizan para calcularla la edad de jubilación se retrasa por tanto todo el mundo va a cobrar dos años menos de pensión

cuando la inflación media de los últimos quince años ha sido del dos coma cinco

entre las dos reformas la pensión se ha reducido en algo más del treinta y cinco por ciento es una cuestión de mala gestión es una cuestión de modelo

absolutamente diferentes una mala gestión que encierra una serie de problemas por una simple cuestión de enfoque

la gran mayoría de los empleos que se crean no son dignos son empleos temporales parciales y los salarios muy bajos hace pocos días los medios de comunicación publicaban que en araba bizkaia y gipuzkoa las personas que han accedido al mercado en este último año han tenido que firmar una media de tres coma seis contratos al año por no hablar de las bases de cotización son muchas las personas que solo pueden pagar la mínima por tanto la primera cuestión a abordar sería crear empleo pero sobre todo empleo y eso es precisamente lo que no se está haciendo eta sortzen ari den enplegua oro har lotsagarria izaten bada are gehiago da gazteen edo

para ejercer de cuidadoras cuidadoras de sus descendientes o de personas dependientes que tienen a su cargo mujeres que realizan cuidados y además tienen un empleo

doble labor y peor cotización menos ingresos y en un futuro menos pensión y más aún en el caso de las empleadas del hogar

además de todo el trabajo remunerado a tiempo parcial el ochenta y cinco por ciento está hecho por mujeres una vez más tenemos que recordar que en este caso

el estado por tanto gestiona una competencia que

en buena parte pero además lo están haciendo de una manera nefasta hay que recordar que no es la primera vez en la legislatura que euskal herria bildu

y también es justo recordar que hace poco más de medio año llegó a este parlamento una iniciativa legislativa popular avalada por miles de firmas pidiendo

está pidiendo en este pleno una iniciativa a la que todos los grupos de esta cámara excepto euskal herria bildu le dieron portazo con nocturnidad y alevosía en las puertas del parón navideño también es justo recordar que solo hace un par de meses el pnv firmamos un acuerdo donde denunciábamos la no materialización de la transferencia del régimen económico de la seguridad social y en ese acuerdo que nosotros

apostábamos por un sistema de protección social público que garantizase unas condiciones de vida dignas incluyendo las pensiones y decíamos

que la seguridad social se desarrollase legislativamente se ejecutase y se gestionase desde las instituciones públicas vascas cuanto antes

transitoria que garantice unas condiciones de vida dignas es decir unas pensiones de jubilación decentes hasta gestionar de una manera completa

de pensiones cuatro años de plazo para crear nuestro propio sistema por lo tanto nuestra propuesta está basada y fundamentada en lo que en este parlamento

eh bildu firmamos hace tres meses a pesar de que ahora los mismos que lo apoyaron entonces parece que hoy vayan a rechazarlo seguramente

ha emitido sobre nuestra propuesta de ley a pesar de que no sería la primera vez que el grupo que sustenta el gobierno

baino baxuagoa da el gobierno en su criterio también nos dice que nuestra propuesta carece de seguridad jurídica porque vulneraría

zehazki beraz hor guk ez dugu ikusten bateraezintasunik y por último el gobierno en un cuarto punto vuelve a caer en ese mismo mantra la autocomplacencia nuestro sistema de protección social no tiene parangón

porque ahora mismo este sistema está cuestionándose por muchos aspectos el decreto de las ayudas de emergencia social se debería de estar modificando a propuesta de este parlamento para proporcionar mayor asistencia mayor cobertura

del mismo lanbide la intermediación laboral y los objetivos que se recogen en la ley de garantía de ingresos

por tanto no creemos que precisamente ahora podamos afirmar tan claramente que nuestro sistema de protección social es inigualable y que parece que con eso ya tenemos suficiente de alguna manera el criterio del gobierno en ese cuarto punto viene a decir

un buen sistema otros están peor no nos vengan ustedes con ocurrencias que ya estamos haciendo suficiente la propuesta que hoy debatimos es una

abierta básica sencilla pero clara y precisamente lo hemos presentado de esa manera para facilitar el consenso para posibilitar un acuerdo y para dejar la puerta abierta a las propuestas del resto de partidos

con el propósito de lograr nuestro objetivo un objetivo que esperábamos que hubiese sido compartido pero ni siquiera nos van a dar la opción de debatirlo nosotras y nosotros no tenemos duda de que la propuesta es viable es posible y buscando las vías de financiación adecuadas porque las hay no tendría que haber ningún problema para poner en marcha esta medida transitoria que ayudaría

creemos por tanto que se trata más de una cuestión de voluntades incluso de valentía laburbilduz hau da gaur egun dugun egoera

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señoras y señores consejeros señor lehendakari afortunadamente tal y como señala eh bildu en la exposición de motivos de su iniciativa en el estado español es decir en la legislación básica y el régimen económico correspondientes a la seguridad social es competencia exclusiva del estado por lo que los elementos fundamentales que caracterizan el sistema de pensiones están en manos del estado consecuencia de ello efectivamente los pensionistas de álava y gipuzkoa están incluidos en el sistema general del estado y a consecuencia de ello sufren sus carencias

del mismo modo que por poner un ejemplo los alaveses sufren o disfrutan de las decisiones políticas del gobierno vasco que les afectan

no por ello van a pedir la independencia respecto de euskadi o la asunción de determinadas decisiones que pudieran romper la igualdad entre los ciudadanos vascos al menos no lo haríamos nosotros lo que pretenderíamos hacer sería corregir esas decisiones del gobierno vasco

ni tampoco la insumisión a las decisiones tomadas por el gobierno vasco y tampoco fomentaríamos decisiones políticas que pudieran romper la igualdad

que el sistema de pensiones sea único es algo enormemente positivo para los ciudadanos como hemos explicado y argumentado en innumerables ocasiones en este

es que hayamos padecido gobiernos de españa que se hayan mostrado insensibles a las necesidades de nuestros pensionistas o que hayan sido incapaces de impulsar las reformas que el sistema necesitaba y necesita para dignificarlo o mejorarlo

recortarlo o que hayan derrochado en asuntos poco importantes mientras se consolidaban pensiones miserables pero que el sistema sea único es positivo es el sistema público de pensiones una materia de estado elemental fundamental y básica en un estado democrático y de derecho

el estado del bienestar es el respeto a esa parte importantísima de la sociedad que no solo merece respeto por lo que ha contribuido sino que también demanda dignidad y tranquilidad el sistema de caja única tiene innumerables bondades la gestión centralizada de caja única es absolutamente recomendable este tipo de sistemas son más seguros cuanto más grandes sean y cuanto más diversificados tengan

de generación de ingresos los sistemas de pensiones funcionan mejor cuanto más universales son es la forma más sensata de gestionar recursos de variados y destinos es la mejor forma de asegurar una institución construida sobre la solidaridad entre generaciones entre territorios entre regímenes y entre diferentes rentas el nacionalismo sostiene que euskadi es autosuficiente para mantener un sistema de seguridad social propio

y que las pensiones en euskadi serían mejores que las actuales si la gestión efectivamente fuera propia y fuera independiente del resto

demagógicas y carentes del más mínimo rigor como hemos explicado

el futuro es ir hacía una seguridad social europea es decir ampliar el número de participantes en el sistema en lugar de parcelarlo en pueblos

el mito ridículo de que ellos gestionarían mejor las pensiones

un mayor ingreso que permitiría mejorar las pensiones vascas lo cierto es que la gestión de la seguridad social es de un contenido técnico altamente

específicamente cualificado para dicha gestión experimentado en la misma y con unos niveles de eficiencia y eficacia inigualados por ninguna administración pública española incluida la vasca por tanto nosotros creemos en un sistema público solidario y unitario para el conjunto del país que incluya y permita eso sí unas pensiones dignas para todos los pensionistas españoles obviamente sin romper la igualdad que garantiza la caja única porque es la mejor forma de garantiza una mayor igualdad una mayor

eh bildu eh bildu nos plantea que mientras se configura el sistema vasco de pensiones que nos arruinaría

a través de una prestación complementaria como el gobierno vasco efectivamente nosotros mostramos nuestro criterio desfavorable y por lo tanto votaremos en contra de esta iniciativa porque está vigente la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social la cual más allá de que pueda perfeccionarse ha cosechado

y porque la proposición de ley carece de la necesaria seguridad jurídica porque vulneraria las normas de compatibilidad en la percepción de prestaciones de seguridad social

en la creciente desigualdad ciudadana que impera en el conjunto de españa por todas estas razones votaremos en contra en fin mejoremos las pensiones para todos y para todas en lugar de parchear aquí o allá y fomentar la desigualdad

del que somos ciudadanos mejoremos las pensiones para todos y para todas acabemos con los recortes sociales mejoremos el modelo productivo creemos empleo digno y estable esto es lo que nosotros proponemos esa es la vía para mejorar
bienestar de los pensionistas españoles y también la vía para mejorar el bienestar de los pensionistas vascos gracias eskerrik asko maneiro jauna

según la propuesta formulada por el grupo eh bildu hasta la materialización de un sistema propio de pensiones

se asegurará a todas las personas jubiladas de araba bizkaia y gipuzkoa que cobren al menos

se llegará de forma progresiva en cuatro años como bien nos ha explicado la señora blanco es decir propone una propuesta transitoria para llegar al final a ese objetivo que es la creación de un sistema

botoa en cuanto a la forma tenemos que decirle desde el grupo popular que esta iniciativa deja mucho que desear en relación a un texto normativo que se supone que debe

una proposición de ley es decir de una normativa con rango

no es cualquier cosa o no debería de ser cualquier cosa en cuanto al fondo me voy a referir a tres cuestiones a parte obviamente de la inconstitucionalidad de la

nacionalistas que recientemente como ha dicho la señora blanco suscribieron una iniciativa conjunta para encaminarse hacia o poder caminar hacia un sistema vasco propio de pensiones la garantía de las pensiones de los alaveses vizcaínos y guipuzcoanos

solidaridad de todos los españoles es decir el principio de caja única que rige el sistema de la seguridad social

la de los vascos un sistema propio cuando somos deficitarios cómo va a ser garantía de la solidaridad de las pensiones de los vascos un sistema que es deficitario cómo vamos a garantizar las pensiones de los vascos en un futuro con unas cotizaciones

de los trabajadores que no sirven para cubrir los gastos que generamos en euskadi en materia de pensiones señorías quisiera recordarles aquí

y los ingresos y somos deficitarios en el cierre del año dos mil quince en una cuantía de dos millónes cuatrocientos cincuenta mil quinientos sesenta

pero hay que decir aquí que siempre hemos sido deficitarios

diez años éramos deficitarios cuando estábamos en pleno empleo y las previsiones

seremos deficitarios en trescientos o cuatrocientos millónes de euros más sí quisiera recordar aquí también las características de la sociedad vasca

esa población va a ir disminuyendo de forma progresiva en el futuro

en dos mil veintiséis es decir la previsión a futuro es que vamos a ser menos la población adulta de entre veinte y sesenta y cuatro años ha disminuido

somos la sociedad más envejecida la población mayor de sesenta y cinco años llega prácticamente al veintidós por ciento y también tenemos las pensiones más altas

estatal de ochocientos noventa y nueve coma veintinueve euros aquí los pensionistas de lo cual nos alegramos mucho en el partido popular cobramos

señor lehendakari con todos estos datos no es apelar al lenguaje del miedo como usted recientemente le decía

palabras suyas que están en las transcripciones de un pleno hace poco en lo que cuando usted se refería a esta cuestión respondiendo al señor damborenea si no eso no es el lenguaje del miedo señor lehendakari eso es ser responsable

este gobierno que usted tiene el honor de gestionar pentsio egokiak edukitzeko ezinbestekoa da sistemaren egonkortasuna bermatzea

es necesario en primer lugar garantizar la sostenibilidad del sistema a través de reformas que lo hagan viable para garantizar las pensiones en un futuro por eso

han ido encaminadas a garantizar conservar y consolidar el sistema público de pensiones y con su condición de sistema de reparto

a los pensionistas y también a los pensionistas vascos primero la sostenibilidad del sistema depende de los ingresos

más cotizantes a la seguridad social como ha pasado en el último mes de abril

social en euskadi dos mil setecientos sesenta y cuatro nuevos afiliados respecto al mes anterior el mejor dato

del dos mil tres hombre sí quisiera recordar que cuando aquí las cosas no se hacen bien

o recordar cuando se perdieron tres millónes de cotizantes a la seguridad social

por ciento de esa pérdida se debió a la gestión de los gobiernos

al señor zapatero pero es que la verdad la gestión del señor zapatero

muy mala para este país que el partido popular tuvo que arreglar con el esfuerzo precisamente y gracias al esfuerzo de las

los españoles recordar ese déficit de la seguridad social que nos dejó el partido socialista por segunda vez es que cada vez que gobierna el partido socialista en españa

de déficit no iban a aparecer hasta el dos mil dieciocho por otra parte para garantizar las pensiones también

dar respuesta a la previsión demográfica y a la situación económica concreta y eso es precisamente lo que han hecho las reformas del partido popular en una situación de normalidad económica

o más de la cuantía del ipc o por encima del ipc

se asegura es decir que a pesar de que haya una inflación negativa

no van a ver congelada su pensión como pasó como decía anteriormente por primera vez en nuestra historia con un gobierno del partido socialista y siempre habrá una subida del cero coma veinticinco por ciento inork ez du alderdi popularrak bultzatutako

y gracias a las reformas del partido popular va a tener la tentación en nuestro país de volver las pensiones se ha devuelto por lo tanto señorías poder adquisitivo a los pensionistas y se ha blindado por ley

a congelarse también se ha reconocido a colectivos por el esfuerzo realizado hacía la señora blanco una apelación a las madres trabajadoras

con el complemento de pensiones a las madres sí señora blanco es que las mujeres que se retiren a partir

están cobrando entre un cinco por ciento y un quince por ciento más de pensión en función del número de hijos y precisamente el objetivo de esta medida es compensar la pérdida de tiempo de afiliación y de bases de cotización por la dedicación al cuidado de los hijos de las

ciertos partidos con ciertas propuestas

en euskadi se complementan aquellas personas que no llegan a una renta mínima establecida en la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social

que arbitramos en la enmienda concreta que da solución a esa previsión contemplada

la dio el partido popular precisamente para que fuera viable la posibilidad de complementar aquellas pensiones más bajas en euskadi y no fuera recurrida

no estaba en esta cámara pero repase la hemeroteca porque verá las intervenciones y que eso fue así sí le voy a dar la razón en una cuestión la gestión de lanbide deja mucho que desear indudablemente con ciento veintiocho millónes de euros de cobros indebidos una tasa de intermediación del tres coma trece por ciento

y voy acabando señora presidenta ahí sí le voy a dar la razón

más cuestiones a parte que como le decía y voy acabando ya señora presidenta estamos

competencial y como bien dice el criterio del gobierno esta iniciativa carece de la mínima seguridad jurídica que vulneraría las normas de compatibilidad
en la percepción de las prestaciones a la seguridad social eskerrik asko garrido anderea besteen denbora gorospe anderea zurea da hitza

aurre eta gehitzeko más de veinte mil personas

en euskadi con un sistema de protección social que de verdad es referente para otras comunidades para otros países está

que perciben pensiones de viudedad eta zuk hori

eso no es escribir y plantear un texto de manera clara y sencilla para que todos podamos apoyar

de una manera chapucera sin ningún rigor que lo que hace es impedir que nadie

apoyar esta iniciativa porque no es propio de una cámara legislativa no es propio de un parlamento como este dar cauce a una iniciativa como esta que no es más que una mera idea

con una clara intención electoral propaganda

escrita de manera chapucera y no de una manera clara y sencilla eso impide que los demás partidos políticos podamos apoyar dar cauce y permitir que se pueda establecer el debate

no necesitan portazo el sistema de pensiones vasco y las pensiones son fundamentales para la sociedad vasca fundamentales de vital importancia

eso exige que ni se le dé portazo como se le está haciendo en madrid

cuando una y otra vez se está reclamando la transferencia de la gestión económica de la seguridad social como dice el estatuto de autonomía ni el rodillo para aprobar leyes que están cercenando las posibilidades

de nuestros pensionistas y nuestras pensionistas ni tampoco el discurso de la demagogia y el populismo

ni portazo ni demagogia ninguno de los discursos es válido para avanzar con seriedad y con rigor en un trabajo que requeriría

mucho trabajo conjunto mucho consenso y no esto arintasunez egindako ekimen bat sinatu genuena aipatu izan duzu

eta seriotasuna eskatzen du la solidaridad de todos los españoles

y la solidaridad de todos los vascos y de todas las vascas que durante cincuenta y seis años o durante muchísimos años más de cincuenta años han sido aportantes netos del fondo de pensiones qué

olvidado quién ha sido durante décadas y décadas y décadas aportante neto de ese fondo nos habla del déficit de los últimos años con qué se está abonando ese déficit con qué con el fondo que se constituyó

a que las vascas y los vascos durante décadas insisto hemos sido aportantes netos de ese fondo el discurso

deben estar encima de la mesa cuando estemos hablando de un tema

esker egindakoa señora garrido lo que a usted se le ha olvidado es decir que como consecuencia

de la reforma del partido popular las pensiones se reducirán un cinco por ciento por década y se llegará

con una protección del sistema un veinte por ciento inferior al actual esa es la consecuencia de la reforma que ustedes han realizado y además sus reformas están en contradicción con las recomendaciones recogidas en el libro blanco de dos mil doce de la unión europea sobre la seguridad social para europa

de lo que dice el informe de envejecimiento de dos mil doce están en contra van en contra de la estrategia europea de dos mil veinte las previsiones del tratado de ámsterdam de la cumbre de lisboa y del contenido esencial de los

de esa constitución a la que ustedes tan a menudo se refieren gure taldetik berriro esaten dugu seriotasunez

para debatir con usted porque para

los argumentos que usted ha expuesto aquí no le creen ni sus propios potenciales votantes al señor maneiro

porque ha hecho de portavoz del gobierno ha hecho de portavoz del gobierno se ha escudado en el criterio del gobierno y punto y a la señora mendia por lo menos ustedes han debatido hemos debatido hemos hablado con nuestras diferencias

lo que nos sorprende es lo que va a hacer en este caso el grupo socialista cuantas veces nos acusa de que no nos dedicamos a las cosas de comer

estamos debatiendo y ustedes le van a dar portazo por la puerta de atrás en cinco minutos la primera pregunta que quiero trasladarles a todos ustedes es si comparten el diagnóstico que hemos hecho en la primera intervención si consideran que la gestión de las pensiones es nefasta

vascas en su gran mayoría son miserables nos gustaría saber si comparten

nos gustaría saber si también consideran que la mayoría de los y las pensionistas vascas tienen cada vez más dificultades para sobrevivir con la pensión de jubilación que les queda porque sí

y porque con su pensión no solamente tienen que sobrevivir ellos y ellas que estamos viendo muchas casos en los que también atienden a otras unidades convivenciales

comparten ustedes todo eso lo comparten porque si ustedes comparten la visión que eh bildu tiene sobre esta cuestión no entendemos

sí señora gorospe firmamos lo que firmamos no es diferente nuestra propuesta es una propuesta transitoria porque sabemos que lo que aquel día firmamos

y hemos buscado una solución transitoria a cuatro años basándonos precisamente en ese tercer punto de aquello enmienda transaccional y todas las preguntas que se les puedan ocurrir o todas las dudas que tengan hubieran tenido su oportunidad

plasmado en enmiendas a nuestra propuesta de ley podíamos haberlo debatido

en hablarlo en una ponencia porque ya les hemos dicho que esta propuesta de ley

ridícula señora gorospe era básica y abierta a la negociación muy básica sí pero abierta a la negociación porque precisamente lo que queríamos era lograr un acuerdo el partido nacionalista vasco dice no a una ilp avalada por miles de firmas que buscaba

que la impulsaron su estilo es cada vez más asombroso

de ela sobre las cláusulas sociales una propuesta gestada de nuevo en la calle una propuesta que buscaba mejorar las condiciones

parece que ustedes tienen alergia a las propuestas de la ciudadanía porque no les gusta ninguna alergia sarpullidos y temblores en las piernas cada vez que en este parlamento

amplia consensuada y gestada en la calle eso sí ustedes se dedican a responder con un no rotundo pero por otra parte no vemos propuestas señora gorospe

parece ser que ustedes tiene algún texto sobre pensiones y décimos parece porque la conocemos por los medios de comunicación la conocemos

pero aquí cero nada de nada en pocos días volvemos otra vez a iniciar la campaña electoral y seguro que ustedes llamarán a la puerta de esas personas

ustedes llamarán a la puerta de esas personas a las que hoy mismo les han vuelto a decir no

caramelos globos para los nietos y el voto porque propuestas no propuestas no eh bildu ha socializado

y esas mismas personas nos han trasladado que no quieren resignarse que quieren movilizarse que van a seguir peleando y manifestándose como los que hoy están ahí fuera en la calle y que siguen recogiendo firmas nos han trasladado que van a volver a traer esa propuesta al parlamento

por tanto señora gorospe vaya buscando nuevas excusas porque parece que de nuevo se van a encontrar con un problema o vayan tomando antihistamínicos porque su alergia se va a agravar

se sigue movilizando eh bildu va a seguir planteando soluciones desde las instituciones ahora bien hay que admitir que tendremos que

con una propuesta que sea del gusto de sus señorías no olviden que hoy todos

nos retratamos hoy no valen postureos hoy vamos a votar vamos a decidir cada cual sabrá cómo quiere salir en esa foto eskerrik asko

sí muchas gracias presidenta postureo el suyo señora blanco que hace aquí una dramatización de sus supuestos argumentos y sin embargo retira al escaño entre risas como si no estuviéramos hablando de un tema lo suficientemente serio como para darle también una solución que sea efectivamente seria efectiva y posible y usted no ha planteado

básicamente demagogia ha señalado una situación injusta que padecen miles de pensionistas vascos pero la solución que plantea no es viable

no he hecho yo de portavoz del gobierno vasco es posible que con toda seguridad coincidamos en este caso con el voto del partido nacionalista vasco pero algunos de los argumentos son muy diferentes he hecho de portavoz de upyd y he planteado los mismos argumentos que he planteado sobre esta cuestión

las mismas cosas muchas de las cuales en fin no comparte

he señalado por ejemplo que afortunadamente la legislación básica y el régimen económico correspondientes a la seguridad social es competencia exclusiva del estado y he señalado que esto es bueno que esto es positivo para el conjunto de la población creo que esto no lo comparte el gobierno vasco pero es una situación política

por parte de upyd he señalado también que es el sistema público de pensiones una materia de estado elemental fundamental y básica en un estado democrático y de derecho es la base social fundamental que sostiene el estado del bienestar esto también es un argumento sostenido en el tiempo

upyd y he señalado algunas de las bondades del sistema de caja única he señalado que efectivamente una cosa es que el sistema sea positivo y que tiene que ser unitario y otra cosa son las decisiones políticas de los diferentes gobiernos que en los últimos años

por determinados recortes sociales y también recortes en el sistema de pensiones por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar de gobierno o cambiar las medidas que toma el gobierno de españa evidentemente nos afectan a todos pero la solución no es parchear la situación la solución no es fomentar la desigualdad entre conciudadanos la solución tiene que ser mejorar el sistema para que mejore la vida de todos los ciudadanos españoles y también la vida

el bienestar de los pensionistas vascos por lo tanto podemos coincidir en que muchas de las pensiones que cobran muchos ciudadanos vascos son miserables son claramente y deberían mejorarse pero no compartimos lo que ustedes plantean he hablado también de los recortes impulsados por parte del partido popular y del partido socialista

en el sistema de pensiones en lugar de impulsar reformas para mejorar las pensiones de todos y que todos ellos puedan ser dignas han hecho justo lo contrario pero es eso exactamente lo que hay que cambiar las decisiones políticas emanadas del gobierno de españa bien sea del

bien sea del partido popular nosotros queremos incrementar las pensiones de todos queremos que los pensionistas españoles y los pensionistas vascos tengan mejores pensiones tengan pensiones dignas y efectivamente se incrementen todas ellas y especialmente las más bajas

ahondaría aún más en la creciente desigualdad ciudadana que impera en el conjunto de españa y por esto votaremos en contra y lo que proponemos nosotros mejorar las pensiones para todos y para todas en lugar de parchear aquí o allá y fomentar la desigualdad dentro del estado del que somos ciudadanos estos son nuestros argumentos defendidos durante años en este parlamento

no sé si son los argumentos del gobierno vasco son los nuestros aunque en este caso es evidente que coincidiremos en el voto una mayoría de este parlamento
votaremos en contra de su demagógica propuesta nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta sí señor maneiro ante un tema serio propuestas serias y rigurosas como las que ha hecho el partido popular a través de las reformas emprendidas a lo largo de estos cuatro años que precisamente

y que puedan subir de forma mínima un cero coma veinticinco por ciento es que si esa reforma se hubiera hecho antes las pensiones en el dos mil diez y en el dos mil once hubieran subido de forma mínima

y no se hubiera congelado como hizo por primera vez en nuestra historia un gobierno socialista

y gracias a esas reformas señorías el gasto global conjunto de las pensiones en el mes de marzo ha alcanzado una cifra y repasen los datos y gracias a esas reformas señorías la pensión media ha aumentado de forma interanual

los datos señorías queda mucho por hacer indudablemente pero ese es el camino para que nuestros pensionistas también los vascos tengan unas pensiones dignas

las garantías de los pensionistas y las garantías de los pensionistas vascos y restos de españoles es la solidaridad de nuestro sistema

y que lo ha dejado vacío por dos veces consecutivas el partido socialista dejando en quiebra la seguridad social y tengo que recordarle los datos que usted como es bastante minuciosa me imagino que los habrá repasado el déficit de siete mil setecientos cincuenta millónes de euros

esa es la realidad que nos dejó el partido socialista también en el déficit de las pensiones

no se hubieran congelado las pensiones porque eso nunca ha hecho un gobierno del partido popular congelar las pensiones ni a los españoles al resto de españoles ni a los vascos

el principio de caja única sino las políticas que se han puesto en marcha para la creación de empleo esas políticas de las que como aquí no se hace nada y el lehendakari

el gobierno vasco porque tiene herramientas propias que como vemos funcionan como funcionan sí

afiliados nuevos a la seguridad social en euskadi ciento cincuenta y ocho mil nuevos afiliados a la seguridad social en españa esa es la garantía la mejor garantía de las pensiones

más cotizantes y más ingresos en la seguridad social y señora gorospe por un momento me había despistado y pensaba que iba a votar a favor de la iniciativa de eh bildu ya vimos que recientemente porque el objetivo lo comparten el objetivo final de llegar a un sistema vasco de pensiones

pocas semanas suscribieron un acuerdo en ese sentido pero mire la que votó en contra y los que votaron en contra

de asumir la gestión del régimen económico de la seguridad conforme al estatuto fueron ustedes seguramente porque dan por finiquitado el estatuto eso sí todavía no nos han puesto la fórmula la nueva fórmula

de la mesa que liquida el estatuto pero ustedes son los que liquidan el estatuto y no quieren respetar el estatuto en el cumplimiento de sus previsiones también en la transferencia del régimen económico de la seguridad social por lo tanto está claro cuál es el camino

el camino de la seriedad de la rigurosidad el camino de garantizar la sostenibilidad del sistema y de garantizar no solo las pensiones de hoy

sino también las pensiones del mañana a las que tendremos nosotros derecho como las que tuvieron nuestros abuelos eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

lo que nosotros no queremos es mercancía averiada ya se lo dijo el lehendakari lo que no queremos es mercancía averiada que es lo que ustedes pretenden darnos nosotros lo que queremos es que se nos transfiera la gestión económica de la seguridad social

el estatuto eso es lo que queremos y ustedes mercancía averiada es lo que nos están dando esa es la cuestión y por eso nosotros estamos peleando porque nos den lo que nos toca

ley orgánica refrendada por este pueblo hace treinta y seis años y que no están cumpliendo sin rigor jurídico sin rigor económico ninguno sin ningún análisis financiero

del impacto que la proposición de ley puede tener en los presupuestos nada huts

egongo litzatekeen proposamen bat la campaña electoral señora blanco usted sí que ha hecho campaña electoral

puro y duro propaganda dura y ya es triste ya es triste que utilicen una iniciativa de este tipo para hacer la campaña electoral

se le ha olvidado la de la custodia compartida qué hicieron ustedes con eso porque solo se dan cuenta también de la participación cuando les conviene a ustedes

behin eta berriro esan duzuna cada uno verá cómo va a salir en la foto

alderdi serio bat las fotos se puede hacer photoshop se pueden trucar pero la foto real pone a cada uno como es

como es y el pnv va a aparecer en esa foto como un partido serio

ustedes van a aparecer en esa foto como un partido demagógico que ya no apuesta por lo visto por el espacio del gobierno haciendo propuestas serias sino que está en pugna fuerte por el espacio del populismo ese es su espacio y así es como ustedes van a salir en la foto y otros saldrán de perfil

eso son acciones eso es acción eso es pasar de las palabras a los hechos eta hori da

en esta toma en consideración porque entendemos la necesidad de un debate sobre la dignidad de las pensiones pero desde luego no compartimos ni el voluntarismo ni el adanismo ni la falta de rigor de la proposición presentada hoy no podemos dar el sí a una propuesta que suena muy bien

porque hay sueldos dignos que permiten generar cotizaciones suficientes así que bienvenidos al debate pero mal presentada el diagnóstico y la solución

a aquellos que por diferentes circunstancias no pueden tenerlos un modelo que empezó a levantarse hace veinticinco años yo entiendo que la izquierda abertzale se quiera marcar ahora un tanto social porque ha estado ausente

en estos años y algo sabemos nosotros los socialistas de las pensiones en la convulsión económica y social de los años ochenta

para mantener el sistema de pensiones fue un gobierno socialista en españa el que hizo valer lo que pone en la constitución que al llegar a la jubilación todo el mundo debe tener unos ingresos y se hizo para quienes habían contribuido y para quienes no pudieron hacerlo también de forma suficiente un modelo de solidaridad que ha sido por cierto todo un éxito

por mucho que haya quienes quieren acabar con él la mejor forma de garantizar pensiones dignas para los pensionistas de hoy y para los de mañana es que quienes ahora están empleados tengan sueldos suficientes para cubrir todas sus necesidades y para que sus cotizaciones y sus impuestos ayuden a mejorar las pensiones y el principal problema que tenemos en este momento con la rgi no son desde luego los emigrantes

necesita ayuda social por cierto esto que venimos trayendo los socialistas a debate

algo que también se lo he escuchado a la secretaria general de lab y con la que compartimos diagnóstico hay otra cosa que también nos sorprende de esta iniciativa y es que el pnv se ha opuesto a su toma en consideración siguiendo el criterio del gobierno

porque este mismo gobierno que ahora manifiesta un criterio contrario no tuvo empacho alguno en permitir que se tramitara la proposición de ley de consultas de bildu a pesar

y su flagrante inconstitucionalidad porque a pesar de ese voto contrario el planteamiento de esta iniciativa señora gorospe viene a avalar

que es el de la privatización pura y dura viene a aceptar que estamos condenados a que se precaricen porque estamos condenados a la precarización laboral así que unos pensionistas

de una pensión privada y tienen coincidencias de fondo en esa cuestión el sistema de pensiones es malo según dice bildu también porque es español

en la exposición de motivos cuando dice que hay personas que cobran pensiones leo textualmente miserables porque el estado español ha decidido limitar la capacidad de la comunidad autónoma en esa materia en fin es malo y no funciona porque es español y el estado español como le llaman es el que hace posible que en euskadi se cobren las pensiones medias más altas de toda españa

son más altos y de no existir esa seguridad social española común que algunos quieren romper tendríamos que dedicar una cuarta parte de nuestros recursos es decir todo el presupuesto de educación por ejemplo unos dos mil quinientos millónes para

y las pensiones que se pagan aquí su solución mágica es un sistema vasco separado que para el pnv consiste en la privatización disfrazada de sistema complementario de pensiones y para bildu la ayuda permanente

ni con otros si quieren hablar de cómo mejorar nuestro sistema de protección

pero con pensiones dignas y con un sistema público que lo asegure y ese objetivo se consigue señoras y señores de bildu con derechos laborales y con política fiscal

efectivamente el tema de fracking es algo que ya hemos hablado en infinidad de ocasiones la última vez en el último pleno de control a dos

diré que los acuerdos en sí mismo son siempre buenos porque unen voluntades y pretenden que el objetivo de ese acuerdo en este caso firmado lleve

los acuerdos son siempre buenos cuando las firmas no son envenenadas y quiero pensar que la firma

a la enmienda transaccional es seria como ha dicho la señora gorospe que venga de un partido serio y que efectivamente pretenda

en el tema que hoy nos ocupa que es el fracking y por qué digo esto porque abrimos este debate dejando constancia de una mala noticia que es verdad que algunos preveíamos de la suspensión cautelar de la ley que impide el fracking en euskadi una victoria social que

ganar el parlamento vasco y qué pasa que con esta suspensión cautelar durante cinco meses esta ley permanecerá fuera del ordenamiento jurídico por tanto el levantamiento o no de esta suspensión coincidirá plenamente con la campaña electoral de las elecciones autonómicas otra mala noticia

es lo que ayer comunicó la señora tapia en un foro en el que participó y que este gobierno ha ocultado a este parlamento y a los ciudadanos vascos desde que se aprobó esta ley hace casi un año ha engañado flagrantemente a los ciudadanos vascos y esto a pesar de que hace dos semanas el señor maeztu y yo misma

el señor erkoreka y de ese pleno se podían decir muchas cosas porque ayer la consejera nos dijo que estando en vigor la ley que impide el fracking estando en vigor esa ley que el gobierno vasco dijo que iba a defender su departamento ha seguido con los trabajos para esta técnica para qué

para qué para qué querían seguir invirtiendo dinero de los vascos cuando ya presupuestario con los socialistas les dijo que no había que gastar un duro acaso van a confirmar hoy que la denuncia que hacía aquí la señora lópez de ocariz esa denuncia nunca desmentida del inusitado interés del gobierno vasco de urkullu

entenderán señores del pnv que una cosa son los discursos

los programas electorales otra cosa son los hechos y desde luego hoy queda claro que otra cosa son los votos hoy tenemos que decir que el gobierno del partido popular en ese afán recentralizador ese que demoniza el partido nacionalista vasco un día sí y otro también

pero le recordamos al gobierno ese gobierno del compromiso con las personas al defensor de los vascos

que hay otros partidos políticos en esta cámara que sí respetamos la voluntad social y mayoritaria

no solo para seguir defendiendo la ley sino para que no utilice ni una sola de sus competencias ni un solo euro público en ningún proyecto del fracking ni en euskadi

este gobierno ha engañado una vez más este gobierno que cabalgó la última campaña autonómica bajo el grito de fracking ez llegó al gobierno para poner toda la maquinaria

y no pueden decir que no no pueden decir que no o podían haberlo dicho si las declaraciones de la señora tapia ayer hubieran sido otras pero ella misma reconoció y le puedo enseñar el corte de voz en el que dice que sí han seguido haciendo los estudios y que se ha seguido investigando

en euskadi al mismo tiempo que decía que era esa ley la que iba a defender porque era la ley que el parlamento vasco había aprobado por tanto seguramente después del voto favorable hoy que como digo el voto en sí mismo es bueno porque a un acuerdo más mayoritario apunta que de cara a las próximas elecciones autonómicas le veremos al señor urkullu otra vez con la bandera del fracking ez la señora consejera la señora tapia

la exploración del fracking en euskadi se escudó ante el recurso en el clásico del pnv injerencia absoluta del autogobierno el portavoz el señor erkoreka

y remató este martes diciendo que van a defender la revocación de la suspensión eso dijo este martes aunque el viernes pasado ya nos dijo que bueno

iban a hacer lo que dijeron al principio o lo que dijo la señora tapia ayer esto no es pretender buscar acusaciones al pnv donde no las hay esto es poner blanco sobre negro una cosa dice el señor urkullu

de hacer o no hacer en lo que tiene que ver con el fracking

de los reproches y del victimismo por un lado y la de debates en torno al autogobierno que todavía no sabemos a dónde nos quieren llevar

pues con todas estas ventajas parece fácil que sin más el gobierno cumpla lo que hoy proponemos aprobar

para defender nuestras competencias ante el tribunal constitucional y que una vez que el constitucional ha suspendido de forma cautelar la ley hasta resolver el fondo

ni participe con dinero vasco en ningún proyecto tampoco ambientales

a explotar esta fractura hidráulica si es que efectivamente escuchan al parlamento

en su palabra a los vascos a los que pidió su voto bajo la bandera de la prohibición para acabar como digo haciendo lo contrario una sospecha más que fundada

a distintas preguntas de los grupos como a través de su grupo parlamentario todo lo que hemos conocido hasta la fecha han sido objeciones a poner límites al fracking incluso cuando ha tocado votar en madrid la modificación de la ley de hidrocarburos

con el partido popular ni el gobierno ni el pnv se han creído nunca que tuviéramos competencias para hacerlo salvo en la última campaña electoral de las autonómicas así que es difícil que muestren convicción para defender esas competencias

podría venir como digo de la proximidad electoral en la campaña este asunto estará sobre la mesa y estará en los debates en esta

y en el de las autonómicas y solo el reproche público

han hecho que ustedes cambien el voto hoy o la posibilidad de quedarse solos en función de lo que pudiera hacer hoy el partido popular porque el autogobierno es algo más que hacer lo que ustedes consideran que les favorece es usar nuestras capacidades para ponerlas al servicio de los intereses de los ciudadanos

pero ya no es solo que los ciudadanos lo quieran sino que ustedes firmaron un acuerdo presupuestario con el partido socialista en el que no

el fracking y aun así la señora tapia afirma que ha seguido y pretende seguir haciéndolo el recorrido de esta ley el recorrido de esta técnica

porque en este dos mil dieciséis por primera vez no hay un euro por mucho que el gobierno intentara hacerlo por la puerta de atrás y por eso

el acuerdo es bueno en sí mismo pero ustedes entenderán que ya desconfiamos un poco de él porque efectivamente ustedes los mandatos parlamentarios pues no son muy de cumplirlos por lo tanto esto puede ser titular de un día pero cumplimiento nunca

costó mucho hacer esta ley como ustedes saben costó mucho que quienes proponían la prohibición directa entendieran que

también nos costó explicarlo no sin coste social

nos empeñamos en prohibir las explotaciones de la canteras en zonas protegidas con el pnv también en contra con una cantera concreta

sin permiso y el tribunal constitucional ya nos dijo que las prohibiciones genéricas son ilegales porque contravienen la ley orgánica esa que ya

aquella sentencia del constitucional nos dejó abierta otra puerta

y lo hicimos con una reforma de la ley de conservación de la naturaleza esa modificación que nadie ha cuestionado que pudiéramos hacerlo y esa modificación que consiguió que la cantera de zalloventa acabará con su explotación

la posibilidad de aprobar la ley que prohibiría el fracking en euskadi

y utilizábamos nuestras competencias para conseguir que no fuera una prohibición genérica sino siempre atendiendo a esas competencias que nos reconoce el propio estatuto de autonomía

y nos fijamos en la ley catalana pero no solo en la vía alternativa que utilizaba sino en aquello que incluso había sido recurrido por el gobierno de españa

la semana pasada el constitucional ha acabado suspendiéndolo de ahí la introducción

algo que difería totalmente de lo que planteaba la ley catalana pero como digo miramos

y el recurso para intentar sortear los problemas por eso confiamos en que finalmente en cinco meses el constitucional levante la suspensión y la ley permanezca tal y como este parlamento por una amplia mayoría aprobó pero una vez suspendida que no anulada

habrá que defender esas competencias propias y sobre todo el gobierno vasco deberá seguir comprometido con las personas y no adoptar ninguna decisión que propicie el fracking

y con la claridad de intenciones mostrada ayer por la consejera tapia

que deje de azuzar victimismos y que en atención a la propia denuncia de recentralización que hace de forma permanente combata esa actitud con armas jurídicas que desde luego sabemos que las tiene

sean utilizadas precisamente para impedir que promotores privados

para dar pasos de gigante en función de sus intereses y en contra de los intereses de los vascos que son los únicos por los que debe velar este gobierno dicho todo esto nos encontramos en una situación ciertamente sorprendente porque si la voluntad

estaría reflejada en ese acuerdo que hemos firmado hubieran sobrado todos los debates que hemos tenido respecto al fracking en el último año hubiera sobrado la necesidad de que el partido socialista introdujera la modificación en la ley de presupuestos del gobierno vasco hubiera sobrado las iniciativas que hemos presentado la última semana señor erkoreka pero entenderán señores del pnv que no entendemos muy bien qué sucede con este tema en el partido nacionalista vasco y porqué no terminan de definirse ustedes y de decir claramente qué es lo que opinan

pero que finalmente ante una coyuntura electoral en aquel momento municipales y forales ustedes se vieron en la obligación de modificar el voto y fue el que fue

al fracking pero que luego vemos lo que sucede venimos de un señor erkoreka que nos dice que no tiene muy claro qué va a suceder si finalmente se suspendía que se ha suspendido y si se prolonga la prohibición

o van a aprovecharse de ese recurso del partido popular en españa para poder hacer lo que realmente quieren hacer y peor aún venimos de una situación en la que la consejera

que le ha dado exactamente igual lo que ha dicho este parlamento vasco que ella ha seguido haciendo lo que le venía en gana que es lo que dijo ayer en forum europa por tanto entenderá que aunque celebramos el acuerdo nos preocupa el acuerdo nos preocupa que ustedes utilicen esta cámara para que todos seamos palmeros de su campaña electoral no solo en este tema que también nos preocupa que trate este tema para evitar problemas pero que realmente luego en los despachos acaben haciendo otra cosa por tanto señor carro que sé que usted es el portavoz en esta materia supongo que nos explicará cuál es la posición del partido nacionalista vasco pero

es la que vota la modificación de la ley de hidrocarburos en madrid es la que vota hoy con eh bildu y con el partido socialista de euskadi es la que defiende la señora tapia o

qué es lo que ustedes piensan en este tema porque a mí me sorprende que ustedes el primer punto entiendo que lo firmen porque es la defensa de las competencias y solo faltaba pero que digan que no quieran meter un duro público al

y que nos diga que ustedes van a poner evitar con las licencias con las que participan que no se lleve a cabo esto pues tienen que entender que ya no desconfianza sino

por tanto esperaremos las explicaciones que usted diga y esperaremos que efectivamente eso que dice la señora gorospe de un partido serio sea real y no sea una tomadura de pelo más
para apuntarse un titular en la futura campaña electoral eskerrik asko rojo andrea

el govern catalán acordó este martes garantizar que en cataluña no se utilizará la técnica de la fractura hidráulica o fracking

pese a la sentencia del tribunal constitucional que declaró inconstitucional la ley catalana que prohíbe esta práctica en la rueda de prensa posterior al

la portavoz del ejecutivo catalán neus munté explicó que esta decisión es la respuesta a la decisión del tribunal constitucional de declarar

que prohibía esta técnica de prospección y explotación de hidrocarburos para tomar esta decisión el govern se ampara en el mandato del parlament por lo tanto

de cataluña garantizó que en cataluña no se utilizará la técnica del fracking a pesar de lo que diga el tribunal constitucional en cataluña

aquí en la comunidad autónoma vasca después de la decisión del tribunal constitucional

en un foro y decía concretamente la consejera de desarrollo económico y competitividad del gobierno vasco arantza tapia

si puede retomar los proyectos de fracking que promueve en euskadi cataluña garantizarán que no se hará fracking euskadi analizarán jurídicamente si pueden retomar los permisos del fracking y esa es la realidad

esa es la realidad con la que nos encontramos y hoy nos encontramos

y hoy el pnv firmando junto a euskal herria bildu y el partido socialista una propuesta no de ley que dice que el parlamento vasco insta al gobierno vasco que en los permisos en los que participe el ejecutivo vasco a través de la empresa pública shesa utilice esa presencia pública para impedir

exploración y o explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de la fractura hidráulica o fracking tanto dentro como fuera de euskadi por lo tanto en qué quedamos van a estudiar jurídicamente si pueden reactivar los permisos del fracking o van a utilizar la participación pública

totalmente contradictorio por lo tanto no sé cuál es la explicación a no ser que estemos ante la esquizofrenia electoral

continuamente lo mismo que votan en madrid a favor de la prohibición del fracking votan a favor de la ley del sector de hidrocarburos

lo mismo que van a votar hoy a favor de que no se utilice el fracking dice ayer la consejera que van a

el fracking basta ya de doble mensaje con el fracking basta ya de ambigüedades y de una muy bien medida falsedad

o no porque en el anterior punto hemos podido escuchar a la portavoz del partido nacionalista vasco decir en el tema de las pensiones acusar a euskal herria bildu exactamente de electoralismo y demagogia y nos han pedido un poco de seriedad porque es un tema muy importante para la ciudadanía

pues mutandis mutandi a este tema

déjense de demagogia este es un tema muy serio

para muchos pueblos y para muchos ciudadanos y ciudadanas de este país y para la salud de las personas de este país y déjense de ambigüedades y dígannos fracking sí o no guk oso argi de dekogu eta beti mezu berdina

muy interesante a la espera de que efectivamente podamos comprobar qué es lo que hace el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco en relación a esta cuestión y a la espera también de cuáles son los argumentos del portavoz jeltzale pero

se plantea un debate donde el protagonista absoluto es el partido nacionalista vasco

y eh bildu muy hábilmente han conseguido traer este asunto al parlamento en un momento crucial

el tribunal constitucional ha decidido lo que ha decidido y cuando estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas y por lo tanto todos los partidos políticos pero especialmente el partido nacionalista vasco tiene que hablar claro y tiene que explicar cuál es su posición política y ciertamente el partido socialista de euskadi y eh bildu han conseguido aunque tampoco sé si era lo que pretendían inicialmente firmar una transaccional

del partido nacionalista vasco pero es cierto como decía la señora rojo que la firma de esta transaccional por parte del partido nacionalista vasco es por lo menos sorprendente pero es cierto que el partido nacionalista vasco la ha firmado y por lo tanto se compromete explícitamente a lo que queda reflejado en esa enmienda de totalidad por lo tanto en principio digamos que

y no ha sido coherente hoy firman esa transaccional y se comprometen a lo que se comprometen en esa transaccional en este asunto se entremezclan

por un lado todo lo que tiene que ver con la técnica del fracking que es un asunto que ya ha sido debatido en varias ocasiones en este parlamento es un debate técnico aunque también político y luego todo lo que tiene que ver con la posición

del partido nacionalista vasco en concreto y del gobierno vasco y del propio parlamento vasco en relación a la suspensión cautelar de la ley del fracking por parte del tribunal

que se toma a partir de ese momento y cómo se responde porque ya se ha dicho aunque no de esta manera tan literal pero es cierto que una cosa es que no pueda prohibirse el fracking y otra cosa que su uso sea obligatorio

y el gobierno vasco en relación a la primera cuestión en relación al fracking nosotros hemos explicado cual es nuestra posición en relación a esta técnica hemos señalado insistentemente que todas las fuentes energéticas tienen inconvenientes y obviamente también el fracking como técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales hemos dicho que de lo que se trata no es de prohibir totalmente esta técnica sino de tal y como propuso el parlamento europeo que el fracking se prohíba allí donde su uso implique

años que se trata de que la regulación legal sea exigente para reducir el riesgo tanto como sea posible ya sabemos que ninguna fuente de energía o técnica de extracción

al mínimo en base a estos argumentos nosotros planteamos una proposición no de ley en su momento en el congreso de los diputados hace ya tres años con algunas

económica decíamos que nuestra dependencia energética hace imprescindible la exploración investigación y valoración realista de nuestros recursos

y la viabilidad técnica económica y medioambiental de su explotación tanto de los recursos convencionales como de los no convencionales tales como el gas obtenido mediante fracking o la extracción de metano en capas de carbón dijimos

pueden producir daños medioambientales severos si no se realizan con suficientes garantías preventivas y añadíamos que en nuestra opinión la solución no es prohibir ni impedir la investigación de sus posibilidades y consecuencias sino establecer criterios legales rigurosos para utilizar la exploración y explotación con un daño medioambiental mínimo y reparable decíamos también y lo hemos dicho en esta cámara que no existen fuentes de energías que no tenga algún tipo de impacto medioambiental negativo por lo que

energética es escoger aquellas fuentes disponibles más convenientes en términos de eficiencia coste impacto medioambiental y sostenibilidad en fin todas estas cosas son las que hemos defendido a lo largo del tiempo

la enmienda de totalidad que hemos planteado a estas mociones defendidas por eh bildu y el grupo socialista dicho esto tenemos el otro asunto que es ciertamente el recurso

vasca sobre el fracking y la decisión del tribunal constitucional de suspender esta ley nosotros respetamos la decisión del gobierno de españa de recurrir la ley en base a sus argumentos está

ha presentado una serie de argumentos y por lo tanto ejerce su derecho a recurrir una ley que considera vulnera la constitución española y también respetamos la decisión del gobierno vasco de defender la ley política y jurídicamente y respetamos como no podía ser de otra manera la posición política de este parlamento en relación a esta cuestión en todo caso sí que décimos lo mismo que en cuando debatimos

hay que respetar las decisiones del tribunal constitucional dicho esto ciertamente como decía al principio la

y en todo caso es mucho más clara que la intervención realizada por el portavoz del gobierno hace algunos días en esta cámara cuando se le interpelaba sobre la cuestión en esta enmienda de transacción se recoge claramente la posición política de estos tres grupos están en contra del fracking se pretende defender la ley del fracking ante el tribunal constitucional se insta al gobierno vasco

impida que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica del fracking y se insta al gobierno vasco

en futuros ejercicios presupuestarios por lo tanto yo creo que la transaccional es clara el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco

a todo esto por lo tanto el partido socialista de euskadi y eh bildu hay que reconocerlo han arrancado un compromiso claro del partido nacionalista vasco en contra del fracking esto creo que es un hecho evidente por las razones que sea el partido nacionalista vasco asume esta transaccional bien porque se la cree bien porque estemos en campaña electoral pero ha firmado lo que ha firmado veremos si en el futuro es coherente con lo que hoy ha firmado y en todo caso

la voz del portavoz nacionalista para que explique concretamente la posición política del partido nacionalista vasco nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

rojo andrea bakarrik falta zaizuna

hori falta zaizuna esatea y escuchando sus discursos cada vez me reafirmo más que con este tema es un tema que hay que tener muy bien atado jurídicamente

estuvimos debatiendo esta ley y tuvimos hace casi un año este debate sí que queríamos todavía más reforzamiento

por cierto el comité científico que hoy mismo

al gobierno catalán le está asesorando para que deje de utilizar esta técnica del fracking el mismo comité científico que ustedes se niegan y se negaron a meter en esta ley al igual que la moratoria porque dejábamos un campo más abierto para que

pero lo cierto es que necesitamos atar muy bien jurídicamente esto y me alegro también muy bien de las palabras del señor maeztu de que cree que esto es un tema muy serio para este país

pues la próxima vez que haya una ley sobre este tema y haya tres comunidades que se los hayan cepillado permita el solicitar comparecencias de la misma manera que en aquella mesa las anuló

también es una pena que en estos seis últimos meses en el gobierno central

las últimas votaciones que ha habido en esta línea con el tema del fracking el único que ha votado en contra ha sido el partido popular y el único que se ha abstenido ha sido ciudadanos

intentar hacer gobierno pero vayamos a los hechos y a la realidad de lo que estamos metidos y fue nada más que salió la foto que fue en la que todo el mundo nos enteramos de que aquí existía fracking y qué era esto de fracking

el señor lópez a un lehendakari en kansas hablándonos de sesenta años de parabienes de gas para este país

de gobierno que para conseguir esos sesenta años eran necesarios según las dos formaciones geológicas y la comparativa entre mil y dos mil pozos y eso es lo que siempre negó

en esa tesitura y por eso estamos mientras ustedes señora rojo después de que el catorce de octubre del dos mil once

todavía el año pasado el ya no presidente del congreso y no quisiera decir las palabras que no dijo en la radio el secretario de acción política esto fue el once de marzo del dos mil quince hace poco todavía decía que no cree que su gobierno se equivocase entorno al fracking e insiste que con riesgo medioambiental cero desaprovechar sesenta años de gas no sé quien está en disposición de hacerlo

y como este mismo portavoz estaba en el dos mil once y estaba ahora el catorce de octubre del dos mil once cuando usted hace la interpelación

en el diario de sesiones de octubre del veintiocho de octubre y el consejero unda le dicen y es aquí uno de los grandes problemas aparte de que usted declina por hacer el parabién de lo que era este sistema y aquí hay un dato importante de porqué la consejera está ahora diciendo lo que dice dice el consejero unda a partir de la concesión se negoció el acuerdo de operación conjunta con las empresas geico y cambria

y que regirá las relaciones entre socios para explotación del gran enara

de tal manera que dependemos de este convenio firmado por ustedes eso es otro hecho y otra realidad que este país tiene que seguir adelante

nos hablaba de autogobierno bueno también quisiera yo creo que es importante también en este tema y en este periodo es cómo

aquí en euskadi se perdió la licencia social y se perdió la licencia social porque nos hablaban de un parabién de sesenta años de gas aquí pero no se hablaba de las consecuencias y cómo había que conseguirlo e incluso a este propio parlamentario que es lo de menos se le engañaba cuando preguntaba hasta en los productos químicos y año tras año iban diciendo unas veces que había que utilizar betex que son los productos cancerígenos de tolueno y al cabo de unos meses ya se decía en otra comparecencia que no

y en la obtención de los permisos también en el dos mil ocho este partido

nada más que llegaron los socialistas al gobierno cuando pidieron documentación complementaria

dijeron es no no quince pozos no vamos a hacer como solo vamos a hacer uno concédamelo y se lo concedieron y ahí está el histórico de cómo en esos tres siguientes años según iban consiguiendo un permiso iban pidiendo de uno en uno hasta nueve

de todos estos hechos es lo que tenemos y esa es la realidad que tenemos con esa licencia social que tenemos perdida con este tema y también es claro que aquí tenemos un largo histórico en la investigación de este país

o que esta misma empresa shesa que tan mal estamos poniendo ahora mismo intentando explotar un yacimiento de gas natural convencional por cierto para obtener la energía

que todos necesitamos pero una cosa es la obligación de la investigación que tiene un gobierno

el precio que tiene que pagar por ello porque hay que investigar sí tenemos unos permisos que queremos que sigan en poder del dominio público y no en manos privadas

no es la apropiada y por eso pedimos esa moratoria de cinco años y por eso seguimos siendo coherentes

mientras usted estaba lavando los parabienes ese

y lo único que le dije en este punto del gas natural lo que le pediríamos desde el partido nacionalista vasco es que sea prudente señor consejero

es lo que hemos estado trabajando todos estos años pero hay una serie de hechos que están ahí que hay que tener en cuenta a la hora de indemnizar o de pagar cualquiera de estas historias

de que también ese discurso esto se considere un tema serio para que podamos debatir tranquilamente sobre este asunto con rigor y con disciplina y no poner el grito en el cielo porque este compareciente pediría siete comparecencias para analizar este tema algo cuando teníamos

y que incluso cuando pedimos a un profesor de la universidad que coincidimos en el mismo personaje bildu y nosotros nos dice que es que no quiere venir

ya sabemos que revuelo había aquí es decir que ni tan siquiera teníamos esa ayuda jurídica y se denegaba esa historia y no me voy ahora a meter

si esta o cualquiera de esas otras o del número de comparecientes que ha pedido uno u otro

es importante y estamos totalmente de acuerdo con esta línea es decir yo no quiero perder esos

es utilizar esta técnica pero sí que quiero seguir investigando ya habrá otras técnicas u otras historias pero sí que tengo que dejar la posibilidad pero quién me dice a mí

en que yo con un triste boli o con un rayo láser sea capaz de hacer así y extraer la energía de los enlaces del carbono o cualquier otra historia tenemos que seguir estando abiertos pero ojo por eso lo he dicho no a cualquier precio y con esta técnica no y eso lo hemos dicho antes ahora

gracias señora presidenta buenos días consejeros señorías

utilizo este turno para fijar la posición del grupo popular ante las

precedidas de la interpelación donde francamente y una vez leídas y releídas

gobierno que bueno tiene concedidos unos permisos y en la respuesta ninguna mención es habitual desde luego que el señor erkoreka ya utiliza por costumbre en esta cámara cual diputado modular del digo al diego y del diego al digo en función de

o qué quiere desviar olvidándose que es miembro de un gobierno y que un gobierno debe venir a esta cámara a contar

y a decir la verdad y señor carro yo mire si de algo estoy satisfecha y orgullosa o por lo menos satisfecha no sé si orgullosa de haber votado a un lehendakari que nos contó la verdad

nos contó la verdad cosa que usted la llevaban ocultando mucho tiempo fíjese que si la llevan ocultando que el señor erkoreka en la interpelación lo reconoció

yo agradezco a un gobierno que me dice la verdad

cosa que ustedes no hacen cosa que es muy habitual en los miembros de este gobierno que ya tienen rasgos muy comunes que delatan cuando hablan no se ajustan a la verdad por lo tanto agradezco que me contasen la verdad porque no sabíamos absolutamente nada esta cámara desconocía por lo tanto como le digo yo quiero un gobierno que me diga la verdad que no module porque el señor erkoreka viene aquí con tres conceptos jurídico

y el político y dependiendo de lo que quiere desviar se centra en uno y en otro y las interpelaciones solo habló de un tema jurídico

absolutamente nada de la opción del gobierno qué piensa hacer el gobierno cuando es

en esto por lo tanto como digo el señor erkoreka no se

en esta cámara desde el grupo popular siempre hemos rechazado el falso

recuerdo aquella primera iniciativa en esta cámara en febrero del dos mil doce hemos mostrado la preocupación por cómo se regulaba la actividad del fracking teniendo en cuenta

a la orografía del terreno a la situación y ubicación de los permisos concedidos a qué pasaba con los residuos que se generaban y acuérdese de aquella

por lo tanto creo que hemos sido respetuosos con la actividad pero también teniendo en cuenta cuál es el territorio y las zonas donde se va a hacer porque hoy mismo tenemos un permiso de un pozo donde sería imposible hacer un almacén agrícola y se puede hacer fracking y eso no lo entiende el

eso es una auténtica barbaridad por lo tanto algo hay que hacer pero este gobierno

a lo que es competencia de él y puede y debe darla y es su obligación por lo tanto nosotros como grupo popular lo que hemos

que primero hay que ver dónde es la ubicación cuál es el entorno cuál es la orografía y hacer unos informes medioambientales ajustados al entorno donde está

permiso concedido por lo tanto siempre apostado por explorar y explotar los recursos energéticos que estén a nuestro alcance pero no de cualquier manera no todas las zonas pueden acoger esta actividad y entendemos desde el grupo popular que es necesario proteger aquellas zonas más sensibles y luego nos encontramos que el pnv hace un mes en madrid vota

que se suspendan las prospecciones ya previstas que se prohíba el uso de la fractura hidráulica pues vengan aquí y háganlo pero es que claro ustedes cuando van a madrid van de guays votan

pasan pancorbo se colocan la txapela a tres roscas y se transforman entonces vienen aquí y ya

ni saben o no quieren decirnos lo que van a hacer lo ocultan hacen lo contrario de lo que votan también en esta cámara

no ninguna no porque han incumplido muchas de las cosas que se han votado aquí entonces

si llevan tantas que no han cumplido pues no les creo ya lo siento yo quiero decirles que mire

cuando tenía que ser y donde tenía que ser este debate es un debate

empezó a mover los hilos pero no lo hizo porque lo ocultó y hoy el fracking está parado ha conseguido

el barril de petróleo baje considerablemente de precio y mientras se mantenga ese precio

no es rentable por lo tanto yo creo que ha sido un éxito donde tenía que ser y en el momento que tenía que ser hoy creo que esa técnica no es ansiada por ninguna empresa

nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa y como les decía

y que realmente haga lo que esta cámara aprueba y que además va respaldado por el grupo político que sustenta al gobierno sería de agradecer que en alguna ocasión lo hagan así nada más muchas gracias

sí gracias presidenta me quiere explicar para qué ha firmado la enmienda

me quiere explicar por qué el partido nacionalista vasco votó como votó la ley no se da cuenta que en su intervención demuestra la tomadura de pelo del pnv con el fracking al país vasco o sea usted viene aquí y me dice que firma la enmienda y dice

que está absolutamente a favor de que el gobierno continúe la investigación vamos a la enmienda punto dos

no lleve a cabo ningún proyecto de investigación explotación y o exploración para qué firma si no se lo cree

usted viene aquí y tiene que salvar el marrón del fracking y le voy a decir más

pero hay una cosa que nos diferencia mucho del partido nacionalista vasco somos capaces de analizar lo que hacemos reflexionar y si es necesario rectificar

y el señor lópez que estuvo en texas no en kansas

es el comodín del público que ustedes aluden siempre cuando no tiene nada más que decir estuvo allí efectivamente se hizo la foto efectivamente continuando los trabajos

con esas actas que el pnv se encargaba de no enseñar y que estaban en lakua por lo tanto el señor lópez es el de la foto y el señor ibarretxe el que lo empezó

reconózcalo al menos que no es que el pnv pasaba por allí les tocó oiga no

con eusko alkartasuna y con el señor madrazo por tanto las cositas como son y el señor lópez va

entiende que ahí puede a ver una posibilidad energética a aplicar a euskadi entendiendo las balsas

se dice que hay que intentarlo siempre que se cumplieran técnica económica y ambientalmente

y una vez avanzado el tema el partido socialista de euskadi decide

no la queremos para los vascos cuál es el problema reconocer que hemos cambiado la posición política ojalá ustedes alguna vez dijeran que en algo tienen que cambiar de lo que han dicho

y de qué pnv me habla del pnv del señor diputado general de álava del pnv de urtaran

en función de la institución que representan pero qué nos están contando es que yo creo que con este tema

no sé si ha sido hábil o no como decía el señor maneiro dan ganas

no se creen nada de lo que firman ustedes quieren seguir apostando por la investigación del fracking ustedes quieren utilizar las competencias

ustedes no se creen nada de esta enmienda transaccional pero tienen que salvar el marrón que les ha caído

pero si su discurso palabra por palabra línea por línea va en contra de lo que dice la enmienda y ustedes firmaron la ley o se abstuvieron en la ley porque había una campaña electoral y ahora tienen otra pero usted no se da cuenta de lo que dijo ayer la señora tapia no es un invento del partido socialista o de eh bildu

escuchando y la señora tapia dijo claramente que aun con la ley se habían seguido con los estudios ambientales que seguirán

eso es lo que dijo ayer la señora tapia entonces qué quiere que le diga pues que al final por cortesía parlamentaria aquí lo que hemos presentado la iniciativa original

pero hombre entendiendo que va a firmar alguien que tiene un compromiso político con el tema y usted tiene un compromiso

y le voy a decir más usted nos habla aquí del proceso de debate de la ilp aquellas las comparecencias no es que no se dieron porque nosotros no quisimos unos no quisieron venir y usted se empeñaba alargar y alargar y alargar y solo faltaba que viniera obama al parlamento vasco a hablarnos del fracking porque

y le diré más yo lo único que pedimos es

porque el país vasco ya ha dicho lo que opina del fracking pues ya que vuelve aquí porque hay un recurso ante el constitucional que es el derecho que tiene el gobierno de españa entendiendo que se invaden sus competencias lo único que le pedimos al gobierno vasco primero

segundo que no mienta y tercero que cumpla los compromisos que adquiere este parlamento mire señor carro no retiramos

por cortesía parlamentaria pero ustedes se merecen que rompamos esta enmienda

léase su intervención porque va absolutamente en contra de cada uno de los puntos de la enmienda y al final en pnv se ha visto acorralado en este tema

porque hasta el partido popular que es quien ha puesto el recurso está en contra de su posición y como bien decía la señora lópez de ocariz no se puede faltar a la verdad

aunque no vayan con la mayoría porque entenderá que nosotros hoy creíamos que ustedes iban a votar en contra

ya no sé qué tiene que pasar respecto al fracking para que ustedes digan claramente qué es lo que opinan de todas formas creo que esto ya no se lo cree nadie

a un señor erkoreka que dice que bueno que ya veremos qué ocurre y a una señora tapia que dice que continuará
por lo tanto tomaduras de pelo ya está bien con el tema eskerrik asko rojo anderea eskerrik asko maeztu jauna zurea da hitza

qué mal cuerpo señor carro qué mal cuerpo me deja su intervención la firma de esta enmienda

y no ha explicado lo que tiene que explicar usted ha salido aquí

por qué firman lo que dice la enmienda y sin embargo

hay una cosa pero que tiene que quedar clara el fracking no lo trajo a este país el señor lópez

el error de sacarlo de un cajón pero en el cajón lo dejaron ustedes en el año dos mil seis ya se firmó dentro del permiso gran enara

cambria y petrichor y eso me deja muy mal cuerpo porque usted eso lo sabe lo sabe perfectamente y viene aquí a intentar poner el foco que ha sido

lo sacó y ustedes luego lo han seguido utilizando pero lo que le decía ustedes

hoy y yo creo que la ciudadanía y la gente que está siguiendo este debate tiene que

por qué ayer la señora tapia ante un recurso que suspende una ley aprobada por esta cámara dice que va a analizar jurídicamente la posibilidad de reactivar esos permisos lo dijo literalmente y por qué ustedes firman hoy un texto que dice que en los permisos que participa el ejecutivo vasco a través de la

van a utilizar esa presencia pública para impedir que se lleve a cabo ningún proyecto de y escuche bien por favor investigación exploración o explotación

que hay que seguir investigando qué recursos tenemos que no

para dejar de investigar cualquier recurso no convencional con la fractura hidráulica con el fracking

otra cosa y no me gusta nada también y me deja muy mal cuerpo el argumento que utilizan y no es la primera vez

el señor consejero toña también con la ley de vivienda hizo una argumentación parecida que tuvimos mucha prisa y que hay que tener cuidado jurídicamente cómo se hacen las cosas qué pasa que cuando a la señora consejera

es que jurídicamente no tiene algo bien atado o a la señora consejera de interior le recurren las ope es que jurídicamente no tiene algo bien atado o cuando pueda darse la casualidad de que nos recurran la ley municipal es que ustedes no han atado o nosotros no hemos atado jurídicamente esa ley

esto es un debate político y el estado está sistemáticamente recurriendo esas leyes para decirnos clarísimamente que no podemos

cómo damos una vivienda a las personas de este país qué hacemos con nuestros recursos naturales o cómo aseguramos la educación o el empleo público ese es el problema no es un problema jurídico señor carro cuidado con esa argumentación porque no nos recurren la ley del fracking

no no nos recurren las becas las ope y muchísimas otras cuestiones eta bukatzeko

andrea bien les vuelvo a repetir y está bien claro

que defiende la investigación pero no la utilización del fracking

de unos permisos que se conceden por espacios geográficos para investigar qué recursos hay luego investigar esos recursos sí con esta técnica concreta que es una técnica concreta la fractura hidráulica el fracking con eso no y es lo que le dice la consejera arantza

y es lo que le digo yo y le seguiré diciendo y a la hora de leer la enmienda transaccional sigan leyendo porque lo que dice es que esa investigación que utilice esa presencia pública para impedir que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación exploración y o explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking tanto dentro como fuera de euskadi

sé que no me expreso bien y seguro que no me lo explico bien investigación sí esta técnica concreta de fractura hidráulica fracking no

efectivamente la foto fue en texas ese maravilloso debajo de un casco blanco y contándonos la verdad como dice

sesenta años de producción porque teníamos un gran recurso vamos a ver que gas

el problema que siempre hemos tenido y por eso desde el dos mil seis

de cada gobierno que es investigar qué recursos energéticos tenemos en ese dos mil seis

es que no sabíamos con una técnica concreta cuánto gas éramos capaces de sacar y qué precio y ese es el que se lanza el señor

se le cae la cantina y ahí produce lo de los sesenta años y nos cuenta la verdad

cuando nos contaba unas cosas de los productos químicos cuando no era capaz de decir cuántos pozos había que hacer y la plataforma estaba continuamente diciéndole que

junto con la formación geológica de aquí la balmaseda si las quería equiparar le salían entre mil y dos mil pozos como luego al final reconocieron que habían hecho el cálculo así

es que le dijo que tenemos dos recursos energéticos uno el gas y otro el agua dulce potable de nuestros acuíferos y que sea prudente y eso es lo que hemos mantenido toda la vida que sea la prudencia y luego señor maeztu

yo creo que tenemos un buen ejemplo cuando se ha trabajado una ley y es la ley de protección de los espacios naturales esa ley

porque hicimos ese trabajo jurídico pero debe reconocer que con el fracking es que no hay nada hay muy poca legislación y necesita un sobreesfuerzo por favor

para una ley que ni tan siquiera existe por ahí y que hay que hacer un esfuerzo hombre que me digan ustedes que para la ley del turismo solamente me han pedido treinta y cuatro yo que pida siete para el fracking por favor

dejemos claro a la ciudadanía dos mil seis número de pozos de fracking

pozos de fracking cero por favor no engañemos a la ciudadanía no

gracias a dios en euskadi y esperemos que así siga siendo y gracias también a la señora lópez de ocariz porque ha dicho efectivamente lo que hemos hecho

estamos promulgando porque esta ley cambie y por qué porque todo depende de unos permisos de investigación y no queremos que los tenga nadie y que venga aquí nadie

ese control público con esa empresa pública y luego hay que contar toda la foto a mí me parece muy bien que seamos eficientes que vengamos en esquí cuatro kilómetros y medio aquí al parlamento a sacarme la foto pero ojo

hay que enseñar a la ciudadanía la foto completa eskerrik asko

egun on lehendakari señorías en el pleno monográfico sobre la estrategia integral

al paro y a la pobreza celebrado en noviembre del dos mil catorce el grupo

propuestas de resolución dirigidas a incentivar el empleo y la formación a propiciar desde las instituciones que ese empleo sea de calidad a reforzar el empleo público y de calidad para nuestros servicios y atender las emergencias de muchos hogares un año y medio después es oportuno recordar las palabras de la señora idoia mendia en aquel pleno

garantía suficiente para vivir con dignidad debemos revisar todas las capacidades que ya tenemos todos los instrumentos en nuestras manos para decidir

seamos conscientes de que esta realidad está entre nosotros que hay una pobreza oculta

y es mejor que ya hoy empecemos a poner remedio porque lo que está en juego

y la dignidad del individuo por eso una de las resoluciones planteadas por mi grupo parlamentario y aprobada

un estudio sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia salarial

sobre pobreza laboral como la de los jóvenes sin emanciparse o los auto empleados de forma que se puedan adoptar a la mayor brevedad

su situación eso se aprobaba en noviembre del dos mil catorce estudio planteaba un tiempo de presentación de seis meses fue a finales del dos mil quince y con seis meses de retraso que el gobierno vasco remitió a esta cámara un documento que denominó estudio pero que no enumeraba ni la definición de conceptos ni la metodología utilizada

en realidad era un informe extraído de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales dos mil catorce donde se señalaba el colectivo de personas ocupadas como una

se veían abocadas a acudir al sistema de protección social precisamente por el incremento de la contratación temporal y de la baja remuneración salarial además asevera ese informe que la inestabilidad laboral existe

de emancipación y esto está influyendo de manera muy preocupante en los procesos de reproducción

un llamativo deterioro entre el dos mil diez y el dos mil catorce que estaba afectando o que está afectando de manera muy seria a la pirámide población y al relevo generacional y esta cuestión es muy importante y no es baladí señorías además sabemos

que viven en hogares donde ninguno de sus miembros trabaja que la tasa de parados de larga duración se ha multiplicado por diez que está surgiendo una nueva forma de pobreza que emana del empleo precario con contratos temporales parciales y con salarios indignos y que corremos el riesgo de que esta pobreza se instale

en estructural definitivamente decía el señor toña recientemente que décima a décima se va logrando bajar la tasa de desempleo en euskadi sin embargo la percepción social es muy diferente porque las últimas encuestas lo reflejan las últimas encuestas reflejan que el paro y la desigualdad son las dos grandes preocupaciones de vascos y vascas el impacto social de la crisis y el desempleo es mucho mayor

y es el perfil de las personas afectadas el que debiera analizar y preocupar a este gobierno porque el desempleo de larga duración y la pobreza laboral afecta mayoritariamente a las personas jóvenes y a los

por eso insistimos una vez más que es urgente poner en marcha medidas de lucha contra la pobreza laboral que favorezcan la contratación en condiciones laborales y salariales dignas la generación de empleo estable y de calidad promoviendo la igualdad entre

y actuaciones de inclusión activa desde distintas perspectivas que faciliten a las personas en situación o riesgo de pobreza el acceso al empleo y que se garantice a quienes trabajan unos niveles de renta suficientes mientras

sea una realidad por eso no podemos ni debemos como insinuó el consejero toña esperar a conocer los datos de la encuesta de pobreza que se presentaran a finales de este año por el simple hecho de comprobar si esta hipótesis se confirma o no se confirma en el mes de marzo euskadi cerró con seiscientos diecinueve personas desempleadas

es cierto que el dato del paro muestra una tendencia a la baja y eso es una buena señal pero ojo porque el dato del desempleo tiene muchas lecturas hoy leíamos en la prensa varias editoriales que recogían distintas aportaciones y distintas opiniones muchas de ellas son muy positivas

bueno hacían yo creo que una reflexión importante que este gobierno también debe hacer o entiendo que estará haciendo porque es llamativo que paralelamente a que esos datos del paro son en este momento el número de personas perceptoras de renta de garantías está mostrando una tendencia al alza se ha situado en situaciones similares a los de hace un año que alcanzó su nivel

que sea el colectivo de personas trabajadoras las que se estén acercando a demandar esa renta de garantía de ingresos pues bueno fruto de esos sueldos paupérrimos que cobran y es llamativo

eskerrik asko presidenta de las ciento cincuenta y dos mil quinientos sesenta y uno personas consideradas como desempleadas solo quince mil lleven menos de tres meses en esa situación

y más de la mitad más de dos años por tanto a corto plazo es urgente trabajar en la reactivación

para poder incorporarlas al mercado laboral ante los empleos que emerjan que puedan surgir y en esto sí que tiene que poner el foco el gobierno y

y evitar esa cronificación en el desempleo hace un mes en esta cámara señor toña aquí presente reconocía la pobreza laboral

expresó su preocupación pero eludió la responsabilidad de su departamento y de su gobierno ante esta forma de pobreza que está haciendo estructural

no dijo qué es lo que van a hacer para minimizarla por eso le interpelamos al consejero sobre esta cuestión porque parece que este gobierno evita hablar de cómo bajo el epígrafe del emprendimiento se están ocultando realidades de autoempleo de autónomos y de falsos autónomos

del autoempleo que oculta que muchos autónomos son trabajadores a los que se despide de una empresa y se les recorta

salarios porque no sabemos qué pretende hacer este gobierno y porque teniendo las competencias no entendemos

porque no se hace ese plan que detecte las falsas contrataciones la pobreza laboral está aquí

que todos tenemos que asumir esta realidad desgraciadamente el propio informe que presentó el gobierno a finales del dos mil quince así lo refleja

además oculta una pobreza aun mayor

y con sus amas y sin posibilidad de poder independizarse o a las personas que trabajan unos pocos meses al año o con jornadas reducidas y trabajadores por cuenta ajena como he dicho antes que son falsos autónomos y nosotros

las competencias en políticas activas de empleo un estatuto a exprimir un concierto económico a aprovechar y entiendo que muchos agentes sociales muchas personas que están dispuestos a abordar estrategias más valientes y más osadas

ha garantizado la integración social y ahora ha dejado de hacerlo reconocía la necesidad de atajar la pobreza laboral a través de distintos programas de activación laboral y a través de toda la política de empleo y las políticas de exclusión y por otro lado también

especialmente de la renta de garantía de ingresos defendiéndola contra los ataques

pero tenemos que ir más allá tengo que volver a recordar las palabras del viceconsejero de empleo del señor blasco decía que a sus hijos

entiendo que lo dijo conscientemente de que eso era así pero bueno si han derivado esas palabras

el propio lehendakari en su intervención en el foro económico de álava hace tres días reconociera a lanbide como herramienta de orientación e intermediación laboral

y sin embargo afirmara que el servicio vasco de empleo en estos últimos años ha estado más volcado en resolver expedientes de renta de garantía de ingresos en los plazos

en el ámbito estrictamente laboral pues bienvenidas sean

para cambiar las políticas y para cambiar todo lo que se está haciendo en este momento en todo el tema de activación laboral y de inserción de formación

queremos que lanbide sea identificada como una herramienta de búsqueda de empleo queremos y es necesario no debe ser de otra manera y todos queremos

porque este gobierno tiene que saber que después de tres años y pico llevan gestionando lanbide y este gobierno tiene que tener sus propias políticas y este gobierno tiene su programa y este gobierno tiene que tener un análisis

si algo no se está haciendo bien habrá que reconducirlo por eso nosotros los socialistas vascos hemos

por activa y por pasiva el tema de la pobreza laboral con preguntas escritas con preguntas orales con una interpelación y con una moción lo hemos hecho en positivo

señorías señor lehendakari señor consejero que estamos satisfechos que nuestra insistencia ha logrado que en este parlamento se alcance hoy un muy buen consenso un consenso mayoritario que

al estrado y explicará su posición hemos firmado todos los grupos y por eso podemos sentirnos muy satisfechos hemos acordado instar al gobierno vasco a que haciendo uso de las competencias autonómicas en políticas activas de empleo elabore en coordinación con los agentes sociales y sindicales una estrategia vasca de lucha contra la pobreza laboral teniendo en cuenta asimismo las propuestas de resolución aprobadas en el pleno monográfico sobre el paro y la pobreza celebrado en dos mil catorce que tengan incidencia directa en la lucha contra la pobreza laboral en segundo lugar instamos al gobierno vasco a que

a través de lanbide intensifique la planificación

de itinerarios personalizados de inserción y de formación para el empleo para lograr un aumento y una mejora en la calidad de la empleabilidad

y dignidad y en último lugar instamos al gobierno vasco a impulsar trabajar y ampliar a través de lanbide la formalización de acuerdos de colaboración y cooperación con cualquier persona jurídica pública o privada cuyos objetivos y actividades sean de su interés en los ámbitos del empleo de la formación profesional

potenciando la colaboración y participación de los agentes sociales y económicos en estos ámbitos tal y como establece la ley tres barra dos mil once de trece de octubre sobre lanbide servicio vasco de empleo termino agradeciendo a todos los grupos su buena

y esperando que el gobierno vasco se ponga a trabajar en el acuerdo alcanzado hoy en esta cámara porque es la sociedad vasca quien así lo demanda eskerrik asko

edo garrantzitsuak diren datuak la tasa de desempleo juvenil ronda el treinta y cinco por ciento

esta casi alcanza el sesenta y cinco por ciento a pesar de estar cada vez más formadas el ochenta y cinco por ciento del trabajo temporal es realizado por mujeres

vascos todas las personas todos los miembros se encuentran paradas el noventa y dos por ciento de los nuevos contratos son contratos temporales

duran menos de treinta días pienso que también es importante recordar

actualmente no tienen ningún convenio colectivo de referencia que regule sus condiciones laborales con condiciones cada vez más precarias con sueldos cada vez más bajos con jornadas cada vez más largas y que el cuarenta y cuatro por ciento de los trabajadores y trabajadoras casi cerca

casi un treinta y cinco por ciento de los demandantes de empleo están trabajando

y el último dato que voy a dar

buscan otro empleo para salir de la precariedad laboral

el término working poors trabajadores trabajadoras pobres ha llegado también a nuestro país personas con salarios tan bajos

que a pesar de contar con un empleo no pueden satisfacer las necesidades vitales básicas

cada vez son más y más cada vez son más las que tienen que elegir entre comer o encender la calefacción por lo tanto hoy no nos sirve con fijarnos

o si está sube un poco o baja algunas décimas es necesario reparar también en todos estos datos

que la precariedad laboral cada vez está más extendida como he dicho al inicio de esta intervención en todos los colectivos y en todas las actividades

gracias señora presidenta egun on guztioi bien el empleo un empleo estable y de calidad y las acciones que lleven a conseguirlo

a todos los grupos políticos no es monopolio de ningún grupo de esta cámara aunque a veces pudiera parecer así en esta legislatura como se ha dicho aquí

hizo muchas propuestas también hemos demandado o demandamos en su día que se adelantase la presentación de la ley de empleo pero no solamente no se adelantó esta ley sino que finalmente

se ha dicho en esta misma cámara por parte del grupo que apoya al gobierno

para la consecución del empleo pero desde luego será mejor disponer de ese instrumento que no disponer de él porque las actuaciones dirigidas a la consecución

y planificadas y por ello nuestro grupo considera que también es necesaria una estrategia global contra la pobreza laboral porque si bien es cierto que tener un empleo es un previo una condición necesaria en ocasiones no es una condición suficiente contra la pobreza y la exclusión

familias que lo pasan realmente mal y también en euskadi tenemos esa pobreza laboral así estudios propios del gobierno vasco señalan que el impacto social de la crisis es mucho mayor de lo que las cifras indican por ese motivo

también este gobierno hagan un trabajo constante transversal y planificado para ir corrigiendo esas desigualdades sociales porque el riesgo de pobreza no es algo nuevo de ahora existe no solo en españa sino también en otros países europeos y no solo existe ahora sino que existe también desde hace tiempo si analizamos los datos

y en el caso de la pobreza laboral es una realidad que afecta a todas las comunidades autónomas de nuestro país y también a todos los países de la unión europea

año de inicio de la crisis hasta el dos mil catorce la tasa de riesgo de pobreza de comunidades autónomas no

alrededor de los cinco puntos de diferencia eso demuestra sin duda alguna que la pobreza se ha mantenido crónica en los últimos años aunque es cierto

es una realidad que existen circunstancias como se ha dicho aquí que agravan la exclusión social de personas aunque estas tengan un empleo así ocurre por ejemplo con el autoempleo

el riesgo de pobreza entre autónomos es mayor que entre asalariados

con la pobreza laboral hay que reconocer y así lo dicen los datos que en euskadi desde el año dos mil nueve la crisis se ha ido comiendo los contratos fijos muchos informes también aseguran que la falta de una formación adecuada es otra de las claves que inciden en la probabilidad de que un trabajador caiga en la pobreza laboral

condiciona este tipo de pobreza los ocupados que viven en lugares

dependientes tienen una situación económica más difícil

la realidad de los datos nos aseguran que los españoles y los vascos no somos muy diferentes al resto de los europeos y que nuestras tasas de riesgo de pobreza

que están por encima y en euskadi también hay pobreza laboral

y la había antes no ha surgido en estos años ni con este gobierno y hay que reconocerlo así como tampoco surgió en españa en esta legislatura sino que ya venía de atrás porque tal y como hemos dicho la pobreza laboral existe hace muchos años aunque parezca que algunos

la memoria socio económica del consejo económico y social vasco del año dos mil quince indica que la pobreza real afectó en euskadi a unas ciento veintisiete mil personas en el año dos mil catorce casi un seis por ciento de la población incrementándose

y esa tasa relativamente favorable es verdad con respecto a la media

por el sistema de protección social que tenemos en nuestra comunidad autónoma que contribuye a reducir esa pobreza como se ha dicho el número de perceptores de la renta de garantía de ingresos ha ido

por lo tanto procurar el acceso a un empleo de calidad es necesario para evitar situaciones de pobreza y para evitar la cronificación en la percepción de prestaciones que fueron concebidas y que siempre han sido concebidas como temporales

e incide en la relevancia de las políticas activas de empleo para el acceso al mercado laboral y el logro

y sobre todo aquí hay que incidir en determinados colectivos más afectados que otros hemos expuesto antes cuáles son los factores que influyen en ese índice de pobreza laboral

reducir o eliminar esos factores de riesgo debe ser el objetivo y

el señor toña cuando contestó a la interpelación que hoy a traído aquí esta moción

pues que lo dijéramos evidentemente no la tenemos nadie tiene una varita mágica y nosotros también reconocemos que la situación es complicada pero hay que trabajar en ella

lo ha hecho el gobierno vasco tiene en su mano competencias e instrumentos para poder trabajar en la consecución de estos objetivos tiene la competencia de las políticas activas de empleo y tiene el instrumento de lanbide

durante mucho tiempo pareció que cuando se tuvieran esas políticas activas todo iba a cambiar que eran la panacea para conseguir una situación laboral absolutamente a la del resto de españa pero la cuestión no es tener las competencias la cuestión es saber gestionar y saber ejercitar esas competencias y en cuestiones laborales como también

va bajando un peldaño cada día las tasas de intermediación son realmente bajas lanbide no es un instrumento que consiga la integración laboral

y detrás de esas palabras lo que está es un reconocimiento expreso del fracaso de las políticas activas llevadas a cabo por lanbide estas

el objetivo que debieran tener que es la consecución de la inclusión activa y en eso es en lo que es necesario trabajar en esa inclusión activa mediante la creación de sinergias

de políticas de empleo más políticas sociales abundar en la coordinación de todos los niveles de gobierno y conseguir la salida de los perceptores de la renta de garantía de ingresos hacia el mundo laboral pero parece que no se está trabajando en ello y que lanbide no está funcionando y es que los datos

de garantía de ingresos valga decir aquí desde el grupo popular que claro que nosotros creemos que tiene que haber un sistema de protección social que tiene que haber un sistema de garantía que

ciudadanos que estén en dificultades económicas que no tengan otros recursos puedan tener recursos para vivir dignamente pero también es cierto que aunque determinados colectivos

y para esos grupos precisamente es para los que se firman los convenios de inserción porque ese grupo está dirigido a salir

y lo que no está haciendo lanbide es precisamente eso conseguir que ese grupo pueda salir al mercado laboral sí le está garantizando esa prestación económica y desde aquí nosotros queremos que se le siga garantizando esa prestación económica

que tiene esa prestación que es que salga al mercado laboral y es necesario por ello

que se les permita su activación laboral que se les permita como digo ese retorno al mundo laboral y para ello son fundamentales itinerarios personalizados hacia el empleo

más estables y de mayor calidad que reduzcan o incluso eliminen los riesgos de pobreza laboral porque como he dicho al principio la pobreza laboral es un mal endémico en nuestra sociedad la situación nosotros reconocemos señor consejero que

problemática no es sencilla y que afecta a más ámbitos que a lanbide que la formación es fundamental para paliar la situación pero que también hay que trabajar con los ámbitos generadores de empleo hay que tener en cuenta que trabajar contra la pobreza laboral lo que conlleva es crear las condiciones para que el mercado laboral se dinamice para que este

que debemos impulsar un tejido empresarial mayor y más competitivo competitivo en términos de investigación y de valor añadido empresas innovadoras donde participen trabajadores más preparados

hay que potenciar que las empresas vengan a euskadi y que las que estén no se vayan únicamente a través del trabajo conjunto de todas las áreas de este gobierno

y es una obligación poner las bases para ello y es lo que creemos que tiene que hacer el gobierno vasco y colaborar también como no con empresas entidades sin ánimo de lucro y de economía social

contenido en esa enmienda de transacción y yo aquí también quiero agradecer la disposición de los otros grupos a la firma de la misma nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea mistoa upyd

sí gracias presidenta nos parecía muy correcta la iniciativa planteada por el grupo socialista hicimos una

fue incorporada a la transaccional y finalmente se ha firmado esta transaccional por

eh bildu y por lo tanto votaremos a favor de esta transaccional no voy a repetir las muchas cosas que ya se han dicho se ha descrito la situación

no voy a repetir los datos que se han dado pero es evidente la situación en la que nos encontramos se ha hablado efectivamente de pobreza laboral de los

del incremento de la desigualdad de los bajos sueldos de la situación de vulnerabilidad que sufren miles de personas del deterioro de las condiciones laborales se ha descrito por lo tanto la realidad tal y como la vemos tal y como es en el fondo y en la realidad y ante eso lo que proponemos nosotros son una serie de soluciones planteadas en esa enmienda de transacción y algunas otras soluciones que los diferentes grupos han planteado desde la tribuna no tenemos baritas mágicas consejero pero tenemos el ánimo dispuesto a seguir trabajando por euskadi y por los ciudadanos vascos creo que esa es la mayor diferencia que tenemos entre usted

esta cámara no basta con echar la culpa a madrid no basta con describir la realidad no basta con que usted señale qué es lo que ha venido haciendo

nuevas propuestas tiene que mostrarse usted animoso tiene que ser capaz de transmitir a la sociedad vasca que usted y su gobierno es capaz de dar la vuelta la situación pero le encuentro

bajo de moral me preocupa señor lehendakari tiene usted un consejero cabizbajo triste

deprimido y lo que es más grave porque nos afecta a nosotros deprimente y dicho esto de verdad con todo el respeto porque creo que es un consejero que es una persona sincera y que dice la verdad pero no basta con eso para dedicarse a la política ser consejero de todo un gobierno vasco es algo

animosa optimista positiva que plantee propuestas que diga vamos a dar la vuelta a la situación no que nos diga lo mal que estamos sino que tome la iniciativa tiene señor lehendakari que animarle a su consejero tiene que intentar hacer un esfuerzo quizás una terapia común

al consejero que es capaz él y todos los que le acompañan de hacer algo más por euskadi y por los ciudadanos vascos porque uno lee

de su interpelación y porque uno es fuerte está acostumbrado ya a situaciones adversas pero sino uno se deprimiría

y ciertamente cuando uno lee lo que

las aporte en este mundo de competitividad alocada de tecnologización radicalizada de automatización de procesos decaerá el empleo y esto nos lo dice el consejero de empleo los datos del último trimestre señalan que

menos si alguien tiene una barita mágica que por favor nos la enseñe decía usted

a la generación o a las generaciones más jóvenes a las mujeres con voluntad de emancipación usted decía que un tres coma dos por ciento de los hogares con personas ocupadas han accedido en algún momento durante los doce meses anteriores a alguna protección social desgraciado malo decía usted nos describía

apuntaba que usted no es capaz de dar la vuelta a la situación

el acceso al sistema de protección es muy superior un quince coma dos por ciento en dos mil catorce que supera claramente el diez coma ocho por ciento del dos mil seis y añadía usted

añadía que la situaciones de pobreza se han incrementado como consecuencia de la crisis y decía hacemos

los signos de los tiempos a veces son los que son nosotros no podemos cambiar el mundo euskadi es demasiado pequeño como para que seamos capaces de cambiar el comportamiento global que nos afecta tan brutalmente sobre todo a los sectores más vulnerables todo esto lo decía usted en esa interpelación

y con baja remuneración aumenten decía usted traduciéndose en mayor demanda de acceso al sistema tiene que animarse señor consejero

tiene que mostrarse dispuesto y no describirnos la realidad solo quiero decir que no podemos tener

de unas materias tan sensibles como el empleo y las políticas sociales que se dedique señor lehendakari exclusivamente a describir la realidad y a apuntar algunas decisiones tomadas por su gobierno

no solo de pesimismo sino de incapacidad e impotencia su falta de garra y de ideas en fin nos preocupa nos preocupa mucho

aunque pueda pensarse que es un milagro que este gobierno cumpla

no le pedimos que cambie el mundo sino que cambie su actitud y usted mismo que tome la iniciativa que plantee medidas que use las competencias de las que dispone

estrategia global que se le pide a través de esa transaccional y que ya fue solicitada hace algunos meses en fin todo esto es lo que le pedimos cambie su actitud

usted es miembro de todo un gobierno vasco usted es importante en ese gobierno y por lo tanto usted tiene que plantear medidas y soluciones en beneficio de la sociedad vasca señor lehendakari tiene que conseguir usted
a este consejero nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

me estaba pareciendo que podía estar hablando usted en algún congreso de upyd más que

pero también es cierto que existen múltiples informes con datos relativos a la pobreza incluso algunos que se refieren a la pobreza laboral y que los datos han de ser estudiados y valorados de forma sosegada y objetiva sin interpretaciones parciales ni interesadas ni fruto de unas circunstancias concretas

para evaluar y conocer la fiabilidad de los datos es necesario informar sobre el método de medición no es lo mismo utilizar un método que otro una valoración que otra no es lo mismo estar en situación de pobreza extrema en situación de riesgo las valoraciones de los datos han de hacerse con rigor no compartimos con usted señora sarasua las conclusiones que expuso el día de la interpelación y que hoy ha vuelto a traer aquí parece

que le parece bien porque los pone en duda los pone en entredicho alegando

y utiliza ese argumento como justificación de su moción

poco riguroso le voy a recordar como también lo hacía la señora llanos que el concepto de pobreza laboral

ni tampoco solamente en euskadi ni mucho menos porque en el estado cuando más creció la pobreza laboral fue el periodo dos mil siete

la encuesta sobre demanda de servicios sociales de dos mil catorce a la que usted también hacía mención y que como bien sabe se realiza cada dos años contemplaba y usted lo ha dicho

y le voy a dar algunos datos que se desprenden de la misma un rasgo muy llamativo de la población en hogares con personas ocupadas en euskadi es que

formas de pobreza real si se comparan los datos de dos mil ocho y de dos mil catorce en términos absolutos el volumen de personas en situación de pobreza real en hogares con presencia de alguna persona ocupada se redujo situándose en cuarenta mil ciento treinta y ocho personas la cifra desde mil novecientos noventa y seis en términos relativos la pobreza real se reduce de forma llamativa entre mil novecientos noventa y seis y dos mil alcanzándose un nuevo mínimo en dos mil catorce con un dos coma cinco por ciento hasta aquí

a pesar de la bajada del número de desempleados de personas desempleadas

es cierto como también lo apuntaba algún otro portavoz

en el hogar de alguna persona con ocupación estable en términos relativos en población en hogares de personas ocupadas de forma estable en la empresa supone una mejora en la evolución más reciente situándose en un doce coma siete por ciento habiendo mejorado respecto a los indicadores de dos mil ocho donde el índice era del catorce coma siete por ciento y dos mil doce donde era diecisiete tres por ciento cinco puntos por debajo en el

datos que nos hacen pensar que vamos por el buen camino sin entrar ni caer en ninguna complacencia porque evidentemente deberemos

mejorarlos el elemento más llamativo es comprobar que en los distintos grupos de hogares con población ocupada insisto con población ocupada la proporción

corresponde al año dos mil catorce evidentemente las condiciones observadas tras la crisis tienen impacto importante en la población ocupada

más a las dificultades de mantener el estatus de bienestar que a una caída importante

la mayoría de las personas afectadas están al margen de las situaciones de pobreza y ausencia de bienestar la mayoría vive en condiciones en las que predomina el bienestar matizado sin embargo relevantes para mantener esa situación de bienestar otro rasgo importante es la pérdida de importancia del conjunto de los hogares de población ocupada entre la población beneficiaria del sistema

es importante remarcar la importancia del sistema de garantía de ingresos que es una gran planificación que sirve para hacer frente a la pobreza

los estímulos para el empleo suponen un gran apoyo ante la precariedad laboral y por tanto ante la pobreza laboral sorprende por otro lado que se pida la elaboración al gobierno vasco de una estrategia de pobreza laboral cuando

alegando que de poco o nada servían baina hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dela esan duzue

estoy segura que todos los gobiernos tendrían su propia ley su propio plan y no existiría pobreza ni laboral ni energética ni de ningún tipo en ningún lugar del mundo el gobierno

que den estabilidad al país para impulsar la reactivación económica y para que se pueda generar empleo empleo de calidad esa es la verdadera lucha contra la pobreza pobreza sin apellidos ni adjetivos hori bai

respecto al punto primero para finalizar es importante dejar claro que el gobierno está trabajando tomando medidas para evitar la pobreza utilizando todos

como son las políticas activas de empleo y el propio sistema de protección social que tenemos los datos así lo demuestran y no tengan la menor duda que el gobierno liderado por el lehendakari urkullu con la ayuda de todos los demás agentes involucrados y también

continuará trabajando para que ninguna persona en este país se encuentre en situación de pobreza

eskerrik asko berriro antes de decir algunas cosas quiero

me gustó entre lo que pienso lo que quiero decir lo que creo decir lo que digo

lo que crees entender lo que quieres entender y lo que entiendes existen nueve posibilidades de no entendernos

que desde luego nuestro grupo tiene claro lo que pensamos y sentimos sobre esta cuestión y por eso hemos elaborado un mensaje claro y con esto le quiero responder a la señora que bueno evidentemente claro que nos unen muchas cuestiones en este tema en el tema de la pobreza

que nosotros los socialistas vascos no hablamos de subsidiar a las personas en el mercado laboral en ningún momento hablamos precisamente de conseguir esos trabajos dignos

que el gobierno vasco tiene que darle a lanbide otra orientación porque esa gestión les corresponde a ellos y aquí no se trata siempre de echar culpas a otros también a veces tenemos que mirarnos puertas hacia dentro y hacer una reflexión de qué tipo de políticas se están llevando a cabo

y hacer una evaluación de si están funcionando o no porque eso es lo que tiene que hacer

eso es así y bueno usted ha dado datos

los datos pero bueno aquí está claro que todo el mundo habla de pobreza laboral y claro que

y lo que está pasando es qué tipo de trabajo o de empleo se está creando y evidentemente el perfil de las personas afectadas

de estos nuevos trabajos precarios y de sus efectos

y esto lo digo a todos los grupos en un terrible problema que vamos a tener que hablar que

porque un país no se construye sin eso podemos crear muchas cosas y muchas variables muchos y hablar de muchas encuestas y de muchos estudios pero tenemos un

tenemos una población envejecida terriblemente envejecida unas perspectivas de futuro difíciles

un problema terrible con la natalidad que vamos a tener que poner sobre la mesa ya

y por lo tanto también la pobreza laboral está relacionado con todo eso porque cuanto mejor sean los trabajos mejor estarán las familias y muchos más efectivos a la natalidad existirán y también en esto tenemos mucho que ver las mujeres

creo que estamos generando en este momento mucha responsabilidad en todo esto y estamos poniendo mucho de nuestra parte en este momento a la sociedad vasca porque estamos trabajando y sacrificando también nuestras vidas intentando corresponsabilizar con nuestras parejas para poder tener a nuestros mayores en casa en sus mejores condiciones y aprovecho a decirlo porque me parecía muy importante con el partido popular pues bueno evidentemente agradecerle la buena predisposición y desde luego no tengo nada que decirle

hemos tendido la mano para llegar a un acuerdo creemos que es un tema suficientemente importante y si a ustedes no les gusta ponerles adjetivos a la pobreza

de derechos laborales de fraude laboral yo creo que sí hay que poner a veces adjetivos porque por desgracia

y existe la pobreza laboral y desde luego que nosotros no hemos puesto en duda los datos hemos hecho otra lectura y lo he explicado aquí y esa lectura existe y creo que eso tiene que

una vuelta de tuerca lo que está pasando en lanbide y desde luego que nosotros no vamos a mirar

evidentemente la reforma laboral nos ha traído hasta aquí y eso es consecuencia de muchas cosas pero nosotros somos competentes en nuestras materias y si euskadi es muy pequeña pues evidentemente con la competencia que tenemos y las que queramos traer habrá que trabaja habrá que demostrar

por nuestra parte nada más y eskerrik asko a todos los grupos eskerrik asko sarasua andrea

posición frente o ante la enmienda

una vez más nuestra propuesta saldrá hoy con otro portazo esta vez ni se va llegar a votar creo porque hay una enmienda transada con el resto de los grupos voy a explicar un poco cual es nuestra posición

si es posible la votación por puntos en el primer punto bueno pues no nos vamos a centra tanto

pobreza laboral o precariedad laboral que es como nosotros lo entendemos y la búsqueda

mediante el empleo nos parece que llega tarde

que no se pone plazo ni nada y se puede quedar

los diferentes agentes sociales y sindicales se recojan aquellas propuestas aprobadas en el pleno monográfico por lo tanto en ese punto bueno pues a pesar de que parece que llega tarde

declarativo de que la legislatura está agotada votaríamos a favor en el siguiente punto

que el objetivo primordial que es de la intermediación el de la orientación el de la prospección no se está llevando a cabo como se tendría que hacer porque es verdad que la

les está comiendo y dar pasos en ese sentido también nos parece positivos

estamos en contra sin embargo del punto tres y el punto cuatro del punto tres

debatido bastante ya en este parlamento hemos demostrado que algunos de los programas que se han puesto en marcha no garantizan el empleo

de calidad hay muchos programas que se han subvencionado con dinero público por lo tanto el pedir al gobierno que continúe con todos estos programas no nos parece coherentes y con respecto al punto cuatro

sí que me gustaría aclarar que creo que viene derivada de una propuesta del grupo popular y creo que en la propuesta

en la propuesta inicial al menos del grupo popular

sí que destacaba el hacer esa colaboración del gobierno vasco

con empresas de inserción de economía social sin ánimo de lucro creíamos que estaba algo mejor porque claro a nosotros desde eh bildu lo que nos da mucho miedo

a externalizar más servicios de un servicio vasco de empleo público que tendría que ser un servicio referente en la intermediación laboral un servicio público y fuerte y bueno el llegar a acordar con cualquier persona jurídica pública o privada sin más parece o por lo menos a nosotros nos da mucho miedo entonces en ese punto votaríamos en contra

volver a reiterar un poco lo que decíamos al inicio

sin realmente haber por detrás un compromiso económico presupuestario potente para tomar medidas desde ya medidas que se podrían hacer

pues bueno consideramos que se quedará en una mera declaración

bien con relación a la enmienda que presentaba eh bildu yo realmente no me he referido a ella porque es que

es una repetición de una iniciativa que se trajo aquí que yo creo que ya todos expusimos aquí en su momento las posturas entonces repetir ese debate pues creo que no tenía ningún sentido y la verdad es que no iba a intervenir en este segundo punto

la buena sintonía que ha habido por haber podido llegar a una enmienda transaccional que esperamos que no sea una declaración sino que sea

esa enmienda lo que pretende es decir que se tienen los instrumentos adecuados que el gobierno vasco tiene los instrumentos tiene el instrumento de lanbide

es utilizarlas y utilizarlas bien para rebajar esos índices de pobreza que como digo

ni de este gobierno ni de este gobierno vasco ni del gobierno del partido popular porque aquí

como dice no le echemos las culpas a otros pero ya ha querido deslizar que es la reforma laboral y es que no es así

en el que dice la pobreza aumenta en españa entre las personas con trabajo pero es que los datos que da

dos mil siete dos mil diez cuando gobernaba de valladolid

economía en dos tardes y la pobreza laboral esa que ahora se le quiere poner ese adjetivo a mí me parece bien que se le ponga el adjetivo pero es que no aparece

tampoco en el programa que ustedes llevaban para gobernar en españa hablaban de pobreza laboral y es más en la época de mayor impacto de la crisis no se activa un plan para la inclusión social el último plan que se hizo fue el dos mil ocho dos mil diez y tiene que ser el gobierno del partido popular cuando llega

elabora el plan nacional de acción para la inclusión social dos mil trece dos mil dieciséis

de la necesidad de avanzar en la defensa del estado de bienestar asegurar la sostenibilidad y sobre todo

es verdad empleos estables y de calidad pero es que hay que decir también de dónde venimos y veníamos de una destrucción absoluta de empleogracias

que decía que la crisis no era una falacia sino que era puro catastrofismo en enero de dos mil ocho que en el dos mil siete decía que estábamos en las champions league de la economía

no eran parados sino personas que se apuntaban al paro eso en febrero de dos mil ocho

recortes y es que yo comprendo

en la oposición cuando gobernaba el señor zapatero que dejó el país como lo dejo se decían

y pronto superaremos a francia como ya hemos hecho en italia y dónde estábamos

en cambio cuando gobierna el partido popular con la cifras que da europa que somos

a pesar como digo de haber sacado a españa del atolladero en el que estaba cuestiones de perspectivas pero como digo yo creo que hemos llegado a una

no sea una declaración sino precisamente un acicate más para poner en marcha el instrumento y las competencias que tenemos para conseguir empleos de mayor calidad
empleos más estables y la reducción de los índices de pobreza laboral nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

salarios dignos más empleo más cotizaciones

comentado por varios portavoces en el punto primero

y estamos de acuerdo pero recordemos y hablemos de los datos en su totalidad también en este caso

es la comunidad autónoma donde los salarios más altos son y donde los índices de paro son más bajos por lo tanto esa apatía

etcétera que se achacaba al sailburu al consejero de empleo creo están fuera de lugar porque los datos demuestran precisamente lo contrario el gobierno está trabajando está tomando medidas y los datos

ahí están y respecto al tema de lanbide de acuerdo en que la gestión de lanbide ha de mejorar no queremos caer en autocomplacencias como lo decía en mi primera intervención pero también hay que ser justo y hay que decir todas las cosas tal y como son y la intermediación laboral en lanbide

alcanza un tres y pico por ciento es de las más altas de europa y está muy a la cabeza del resto de servicios públicos de empleo

no se lo oigo decir a ninguno de los portavoces que utilizan y que hablan de lanbide siempre hablan de lo mal que está lanbide de que no se hace nada y tal

es verdad que habrá que seguir mejorando pero la tasa de intermediación es de un tres y pico por ciento miren a ver dónde encuentran tasas de intermediación mejores eta para finalizar pues claro hay que saber también de dónde

la transferencia de las políticas activas de empleo se vinculó que la mejor forma de sacar a la gente de la exclusión era con el empleo y por eso también se decidió que lanbide

en ese momento y entendiendo que era

pero hágase en un momento posterior porque ya las políticas activas de empleo van a suponer

se negó se negó y se negó y dijo que había que hacerlo todo a la vez

la situación de lanbide está mejorando los datos lo avalan

mejorando y para eso evidentemente necesitamos la ayuda de todos y de todas besterik ez eskerrik asko

buenos días señora presidenta señorías consejera

expresando mi solidaridad con la universidad pública vasca

y por la condena de los ataques que sufre en nombre de las ideas precisamente al centro de las ideas señorías durante cuatrocientos años

a los finlandeses pero nosotros estábamos en otras batallas hoy señorías un adolescente medio de finlandia

habla inglés a la perfección y lee un libro por semana un alumno vasco y el sistema educativo vasco tiene algunos buenos indicadores tiene más de un treinta por ciento de posibilidades de haber repetido curso su competencia en inglés no llega a be uno en el marco de referencia europeo

nunca lee por placer y eso que pisa afirma con rotundidad

entre la lectura que hace un alumno es mucho más importante para su desarrollo intelectual que la relación que pueda haber entre el conocimiento del alumno y su nivel socio económico estamos en otras batallas señorías seguimos estando en otras batallas el mundo está compitiendo por el conocimiento y mientras el aprendizaje es la herramienta imprescindible para el desarrollo no solo del individuo sino de la colectividad pero estamos en otras batallas como digo porque frente a la lomce obligados por la lomce en vez

innovar la aplicación para el menor perjuicio posible nos atornillamos la atornillamos con una herramienta

que no es otra cosa sino la aplicación a la comunidad

de una pedagogía completamente inexplorada completamente no investigada que siendo

como puedan ser el grupo de ikastolas en esta comunidad no tiene por qué ser para todo el sistema educativo vasco en su conjunto por eso señorías nosotros hemos rechazado

en su nacimiento exactamente los mismos defectos que concurren en la lomce de manera inopinada de manera

sin partir de ninguna evaluación diagnóstica nos encontramos con un desarrollo curricular no solicitado por nadie que surge precisamente de un impulso burocrático administrativo

y que viene a ponernos encima de la mesa una pedagogía

que ni siquiera se aplica en bélgica me quedaré ahí de momento

introduce un sistema de evaluación francamente impracticable es que es impracticable ya empieza por separar y dividir la primaria en dos en tercero y en sexto so pretexto de no hacer

dice vamos a hacer lo que dice heziberri oiga y heziberri qué dice

hay que evaluar en tercero y hay que evaluar en sexto

salvo en la metodología montessori para la educación infantil

en general no son aplicables pero mucho menos aplicables son las evaluaciones antes de los diez años no hay ningún sistema educativo más que los raros extravagantes que evalúan a los nueve años pero aquí

algún medio de comunicación así será la reválida a los nueve años dice el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis

que solo afecta a la comunidad autónoma vasca dice que así será la reválida

a los nueve años cuando todo el mundo sabe que a los nueve años una evaluación nunca puede ser un referente del conocimiento de un niño y mucho menos en un sistema educativo bilingüe que como el vasco tiene una gran distancia filológica entre las dos lenguas en las que enseña

tiene una gran distancia no solo filológica entre las dos lenguas sino una distinta instauración implantación una diglosia enorme entre las dos lenguas en las que enseña solo el veinticuatro por ciento procede de un hábitat

la reválida será así a los nueve años mire señorías

pero claro cuando nos vamos a encontrar con las evaluaciones pues resulta que nos vamos a encontrar todas

era donde teníamos una secuencia de siete años

una relación intelectual de cómo se iba evolucionando

pero se dijo a los centros educativos que esa se haría las evaluaciones tal se dice en qué centros se hará está planteado para el próximo curso y se hará en todos los centros de primaria

pero también tenemos la evaluación de cuarto de secundaria

y la de segundo de bachillerato es decir señorías que cuando

pieza como si fuera un mecano por los mismos que la montaron nosotros seguimos bien atornillados aquí

la pregunta es coherente la pregunta es lógica qué va a pasar cuando la lomce sea derogada

qué nos va a pasar a nosotros qué va a pasar con heziberri heziberri permanecerá heziberri se irá

entonces por qué no adelantarnos por qué no

heziberri no ha sido pactado heziberri no ha sido consensuado

ayer ya supimos finalmente que tampoco parece que la confederación de ikastolas esté muy mucho

por tanto quiénes la sostienen quiénes la sostienen quién sostiene heziberri qué utilidad tiene heziberri qué utilidad tiene cuál

para qué si ni siquiera desarrolla las habilidades en las que

las competencias digitales y el conocimiento de idiomas son dos habilidades hoy mismo los medios de comunicación vuelven a llegar al consenso de que son las habilidades que hay que meter en la mochila de todos los trabajadores ahí se deja y el que quiera que haga y el que quiera que no

para todos y para todas ahora solo sare hezkuntza un grupo los de madurez

un trilingüismo que avanzaba con dificultades pero ex aequo para todos pública concertada

con dificultades con evaluación con dificultades con evaluación ahora qué tenemos un

que la concertada lo lleva viento en popa sesenta mil alumnos pero la pública no la pública no claro es que los problemas de la pública señorías

y aún hay quienes se extrañan de que haya

porque ayer tuvimos una buena sesión de la pública también claro cuando a las personas les falta lo elemental les faltan las aulas

les faltan los laboratorios y qué decir de los equipos deportivos de los espacios deportivos sí sí ayer tuvimos eso no me mire señora berriozabal ayer tuvimos eso

pero eso también existen en nuestra educación pública por eso hay que hacer planes estratégicos

para poder moverla porque no habrá calidad no habrá inclusión no habrá

si efectivamente el sistema educativo no mira a quienes están un poco peor y en la escuela pública hay excepcionales profesionales y hay centros públicos punteros pero hay otros a los que hay que ayudar sobremanera por eso señorías

no sé si lo quiere alguien pero dígannoslo retiren estas evaluaciones impracticables y vayamos a hacer un pacto escolar

pacto porque el pacto escolar del noventa y dos dio resultados dio la ley de la escuela pública como resultado y la ley de cuerpos docentes como resultado

tenemos que hacer un gran acuerdo y un gran acuerdo que surja de un diagnóstico de un diagnóstico compartido

que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa hagamos ese diagnóstico y hagamos una ley
que sitúe a la escuela pública en el centro del sistema eskerrik asko

la enmienda transaccional firmada por eh bildu y el grupo socialista pide básicamente cuatro cosas al gobierno vasco o pretende que este parlamento pida cuatro cosas al gobierno vasco por un lado hacer frente de modo activo y con todos los recursos a su disposición a la lomce situar a la escuela como referente el sistema

y la suspensión inmediata de su inaudito sistema de evaluaciones y avanzar en el cumplimiento de objetivos cuantificables de mejora en términos de equidad inclusión y calidad nosotros podemos compartir algunos de estos objetivos

alcanzar los objetivos de equidad inclusión y calidad y estamos de acuerdo con que la escuela pública sea el referente del sistema

ciertamente se cae a pedazos y se va a caer más a pedazos

seguridad y estamos también en contra del plan heziberri dos mil veinte y de su sistema de evaluaciones pero no compartimos otras muchas cosas que se plantean y no compartimos muchas cosas de lo sustancial que se ha defendido ya y que se va a defender a continuación por parte de determinados grupos políticos en todo caso también pensamos que las leyes aquellas que nos gustan y aquellas que nos disgustan deben cumplirse y también

ciertamente todo parece indicar que tiene escaso futuro dado que la representación política por lo tanto está cambiando y la aritmética electoral será diferente en el próximo congreso de los diputados y la ley wert caerá y también caerá

al tiempo preferimos hablar del futuro de las decisiones que se deberían tomar cuanto antes

de educación no basta con criticar lo que tenemos sino que se trata de tomar nuevas decisiones y algunas de estas decisiones que pensamos nosotros humildemente

de totalidad nosotros lo que proponemos es instar al gobierno de españa y a los partidos políticos con representación en el congreso a impulsar de común acuerdo y buscando el mayor consenso posible un pacto por la educación en españa para las próximas décadas para los próximos veinte años

una reforma constitucional para que la educación sea competencia del estado se garantice la excelencia educativa y la igualdad de oportunidades y donde el profesorado sea pieza esencial para la mejora educativa de los alumnos el sistema educativo español no logra hacer que florezca el talento hay muchos menos alumnos excelentes en nuestro país

elevado y aunque no estemos lejos de la media en los resultados globales estamos por debajo del puesto que nos correspondería respecto al tamaño de nuestra economía y así llevamos una década los problemas parecen bastante bien localizados hay que mejora la calidad de los docentes

potenciar la autonomía de los centros e instaurar procesos de evaluación y de control estos objetivos evidentemente valen para cualquier comunidad política y también

afrontaba de forma insuficiente estos retos y renunciaba por completo a resolver el principal problema que tiene en nuestra opinión la educación en españa la desigualdad territorial además de introducir elementos que criticamos en su momento también en el congreso de los diputados

de residencia las diferencias son las mismas que existían en el siglo diecinueve españa está fracasando escandalosamente en reducir esta fuente

al menos en los últimos treinta y cinco años es el modelo territorial del estado que se deriva de la constitución de mil novecientos setenta y ocho la educación principal

es una competencia transferida completamente a las comunidades autónomas el resultado es que tenemos diecisiete sistemas educativos con las consecuencias conocidas y por lo tanto en nuestra opinión el estado autonómico ha aumentado

con la educación unas comunidades autónomas están mejor y otras están peor y esto no se corrige y lo que se trata es de igualar el nivel evidentemente pedimos por lo tanto la devolución de la competencia de educación al estado más formación para el profesorado más autonomía para los centros seguimiento y evaluación más atención a la primaria mayor reconocimiento para la figura de los docentes una formación profesional más atractiva

esto para el conjunto de españa para igualar por arriba el nivel educativo en cada una de las comunidades autónomas ya sé que hay diferencias entre las diferentes comunidades autónomas

pero creo que hace falta una visión global del país y tratar de implementar estas medidas para el conjunto de los ciudadanos españoles esta es por lo tanto nuestra posición política que la educación sea competencia del estado para mejorar la calidad de todos los ciudadanos

la diferencia principal con la situación actual radicaría en los contenidos curriculares que serían básicamente los mismos en toda españa con independencia de la lengua

un currículo unificado tiene como consecuencia una segunda ventaja importante facilitar la movilidad de escolares y profesorado por todo el territorio español en la actualidad

y once leyes diferentes hace que un traslado familiar se complique cuando hay niños en edad escolar en el país vasco o en galicia ya es muy difícil elegir el castellano como lengua vehicular en un centro público para por ejemplo niños que provengan de otras partes de españa y en cataluña es sencillamente imposible incluso entre comunidades autónomas sin lengua oficial hay diferencias curriculares que significan barreras de acceso para niños de otras comunidades autónomas por otra parte el estilo de vida actual y las exigencias de la economía hacen que hoy sea muy habitual que familias jóvenes con niños deban cambiar de residencia

hay que facilitar esa movilidad y la unificación del sistema escolar es sin duda un modo de hacerlo favorecer la movilidad del profesorado también es importante permite optimizar los recursos humanos compartir experiencias

de otras comunidades autónomas el único límite para acceder a un puesto docente debería ser de cualificación por supuesto que para las asignaturas en euskera debe contratarse profesorado que domine perfectamente esa lengua

no debería haber ninguna razón para impedir el acceso de profesorado de otras comunidades autónomas y también de otros países pensamos que esto puede conseguirse con una ley de educación única para toda españa que prevea un porcentaje suficiente de contenidos autonómicos

con el aprendizaje de la lengua cooficial que se ignore

que por una parte se trabaje en el espacio educativo superior europeo para lograr que cualquier universitario pueda cursar esencialmente la misma carrera en cualquier país de la unión europea y en españa se haya destruido el espacio educativo común del nacionalismo y del localismo respecto a la gestión es mejor que siga siendo competencia de las comunidades autónomas porque es seguro que las comunidades autónomas y los ayuntamientos en su caso conocerán mucho mejor las necesidades y los problemas educativos de cada comunidad

cómo reforzar sus medios para afrontar problemas locales decidir si se invierte en determinados programas propios etcétera pero en nuestra opinión el currículo escolar es mucho mejor que lo establezca una ley común una misma ley por lo tanto descentralizada es lo que defendemos una sola ley educativa común para un sistema educativo descentralizado en la gestión abierto y de calidad en fin este es nuestro modelo y esto es lo que pretendíamos decir más allá de criticar

heziberri creo que de esto deberían hablar los principales partidos políticos en los próximos meses esto es lo que pedimos que se lleve a cabo pensamos que esto es lo importante esta es la tarea que pensamos deben impulsar en los próximos tiempos las principales fuerzas políticas nacional por la educación consensuado para las próximas dos décadas que deje al margen las luchas partidistas y sectarias entre los principales partidos políticos que educación sea competencia del estado

apoyo especial a la educación pública educación laica más inclusión más calidad y más equidad para todos

y a heziberri están bien y las compartimos pero pensamos que es insuficiente especialmente en este nuevo tiempo político donde muy probablemente

como el propio heziberri dos mil veinte se caigan poco a poco a pedazos en los próximos meses y los próximos tiempos gracias

erabatekoa eta osoa dugu ppek abian jarritako lege horrekin el partido nacionalista vasco ha estado y está

motivos pero destacaría principalmente tres por un lado que se trata de una ley sin ningún consenso e impuesta que se trata de una ley que invade las competencias de euskadi en materia educativa y que se trata de una ley que no supone mejora alguna para el sistema educativo vasco ni se adecua a nuestra realidad lo dijimos antes de que se aprobara la ley y lo seguimos diciendo ahora

ya hace algunos meses mostró su amplia voluntad

de hecho pidió instó al gobierno vasco a que pusiera todos los recursos necesarios para enfrentarse

manera activa al igual que le pedía la amplia mayoría de este parlamento hori zen legebiltzarrak eskatu zuena eta guk hala jaso dugu gure

y la enmienda y el posicionamiento de eh bildu y el partido socialista tanto en la iniciativa original en la enmienda del partido socialista como en esa enmienda transaccional que ha hecho que eh bildu asuma por completo el posicionamiento del partido socialista parte de una premisa totalmente errónea dicen querer impulsar un amplio pacto y piden retirar los desarrollos curriculares autonómicos de la lomce que equiparan

y les vuelvo a decir que heziberri no es el desarrollo curricular de la lomce la señora celaá y la señora arrondo lo saben perfectamente pero están y además sobre todo en el caso del partido socialista es ciertamente sorprendente esta cuestión porque el grupo socialistas vascos fue el grupo parlamentario que en este parlamento instó al gobierno vasco

si eso es así me puede explicar usted cómo el gobierno español ha hecho un requerimiento al gobierno vasco diciendo todo lo contrario diciendo que el decreto doscientos treinta y seis no respeta lo establecido en la normativa básica estatal y requiera que se modifique me puede usted explicar cómo se puede

venga hacer un requerimiento pidiendo una modificación del articulado es más que evidente que no es verdad que heziberri es la aplicación de la lomce

upydk ere itun bati buruz hitz egiten du upyd habla de un pacto educativo para veinte años y hoy le hemos vuelto a escuchar que lo mejor para todos sería que la educación fuese competencia exclusiva del estado español a través de una reforma constitucional

siempre nos hemos mostrado partidarios de labrar con los consensos más amplios posibles en materia educativa para dar estabilidad siempre nos hemos mostrado partidarios para labrar consensos para acordar una nueva ley educativa que deje sin efecto

el tercer punto de la enmienda a la totalidad que hemos presentado

para poder abordar ese debate en el congreso

que algunos promueven más allá del señor maneiro y upyd alguien trata de vulnerar las competencias que nos corresponden o de dotar de la competencia educativa exclusivamente al gobierno español

es hora ya de cambiar este discurso manido repetido y viejo que trata de

bildu nos propone hoy un boicot a la ley incumplir la ley ser insumisos a la ley retirar no solo la ley de la lomce sino retirar todos los decretos del gobierno vasco el plan del gobierno

que convirtamos absolutamente en blanco los últimos cuatro años

a esa posición se suma a la posición de incumplir la ley del brazo de quienes están hablando de imposiciones del estado y que no solo

de corte nacional simplemente porque están en contra de respetar los mínimos principios democráticos que creo que

en el discurso y en el debate educativo cuál es el concepto de democracia si no me gusta una ley no la cumplo miren el gobierno del partido popular entre mil novecientos noventa y seis y el año dos mil hasta el dos mil dos aplicó la logse y la desarrolló

que no se consensuó con nosotros además presumíamos que no iba a tener resultados

a respetar la democracia y a cumplir las leyes en dos mil dos aprobamos una ley que cuando iba a comenzar su aplicación en el dos mil cuatro llegaron los socialistas y la derogaron

no se llegó a aplicar seguimos con leyes socialistas aprobaron la loe

que dos años después arrojaba récords de fracaso escolar

el doble que la media europea nosotros pensamos que no podíamos seguir así y nos presentamos a las elecciones con un programa muy claro reformar

una confianza mayoritaria de la sociedad española una confianza mayoritaria de la ciudadanía que ustedes desde luego no están dispuestos a respetar porque nos tenemos que

la gente cuando vota lo hace desde marte

y que le da mayorías parlamentarias son ciudadanos con los mismos derechos que los que les votan a ustedes nosotros podríamos haber hecho lo que hicieron los socialistas

y que quedase en aplicación la ley de calidad del partido popular pero no lo hicimos porque entendimos que lo que había era que aprovechar

aquel planteamiento de pacto por la educación que trató de impulsar el ministro socialista gabilondo

no de liquidarla sino de modificarla detectar cuáles eran las deficiencias y poner encima de la mesa medidas que pudiesen corregirlas

de ese pacto social y político por la educación que impulsó el

pero desde el principio ni siquiera esperaron al debate parlamentario los socialistas dijeron que no

dos años antes iban a aceptar una propuesta educativa que viniese de las manos del pp por supuesto nadie en este país tiene derecho a opinar

bien ese es su planteamiento de la búsqueda delconsenso nosotros entendimos que no podíamos quedarnos parados la señora celaá viene aquí nos hace un balance absolutamente mediocre de la educación nos dice lo lejos que estamos de los países del centro de europa y del norte de europa lo mucho que tenemos que hacer y lo que nos plantea es

que retiremos aquí todos los decretos y que volvamos a la situación que nos llevó a esa situación de fracaso oiga pero cuál es su propuesta alternativa además de derogar la lomce porque ustedes

ni un solo planteamiento que se apoye en argumentos técnicos o pedagógicos ni uno solo

solo prueba su sectarismo eso que nos dijo la consejera

en esta región la educación tiene solo un color el rojo de los socialistas ese es el color de la educación en castilla la mancha y esa es su manera de entender la escuela

al servicio de su estrategia política como hacen los nacionalistas pero yo creo que ustedes lo que tienen que hacer aquí socialistas y nacionalistas

o solo cuando les conviene si van a ser insumisos a la ley

y no buscar subterfugios o ir a remolque de los discursos de bildu porque ustedes se ven arrastrados por supuesto por los discursos de bildu y quieren plantear que ustedes se acomodan la lomce pero lo hacen a su manera pero ustedes tienen que decir

si las familias quieren conocer cuál es el diagnóstico de la escuela vasca

que conozcamos que tengamos un diagnostico claro para poder mejorar y no hay manera de mejorar si no tenemos un diagnóstico claro y unas evaluaciones de diagnóstico aquí el problema que plantean una evaluación diagnóstica con nueve años y en cambio con diez está bien

oiga pero es que ese no es un argumento que se sostenga porque ustedes están en contra porque se haga a los nueve años pero a favor de que se haga a los diez

y a los dieciséis y también en contra a los dieciocho oiga ustedes están en contra de todas las pruebas de evaluación solo están de acuerdo a los diez y a los catorce porque se les ocurrió a ustedes oiga pero vamos a ver podremos llegar a un entendimiento a un acuerdo

veinticuatro países de la unión europea han puesto las pruebas de evaluación que nosotros planteamos y usted sabe perfectamente y no tiene que hacer demagogia

no tienen efectos en la calificación de los alumnos no tienen efectos académicos y simplemente son pruebas

y qué es lo que tenemos que mejorar yo creo que es un discurso contradictorio

como decía nosotros creemos que hay que superar el debate lomce sí lomce no

flexibilidad a la hora de aplicarla hemos tendido la mano para poder abordar una nueva etapa a nuestro país tratando de buscar un pacto por la educación lo apuntaba

que han presentado una moción nosotros estamos desde luego abiertos a un pacto por la educación en españa creemos que debemos explorar acuerdos oiga modifiquemos

busquemos consenso oiga pero es que nosotros formamos parte tenemos que formar parte de este consenso

representamos a millónes de españoles el consenso no se trata de decir oiga

de quién del populismo este de corte comunista que lo que plantea para la educación es cerrar los colegios concertados eso es lo que nos tiene que decir los socialistas eso es lo que nos tienen que decir

quiere construir del brazo de los que quieren cerrar los colegios concertados por ejemplo oiga eso es lo que nos tiene que decir no buscar subterfugios para

y nos podemos poner de acuerdo oiga nos tiene que decir ustedes con quién quieren construir los consensos

yo creo que nosotros estamos demostrando que estamos abiertos a ese diálogo tenemos que avanzar

creemos que el sistema educativo está mejor que hace cuatro años oiga nos encontramos

con una tasa de abandono temprano de casi el veintisiete por ciento señorías hace cuatro años casi el veintisiete por ciento de abandono temprano este año estamos en el diecinueve coma nueve señora presidenta hemos reducido la tasa de abandono escolar de fracaso escolar en seis puntos pero debemos seguir avanzando necesitamos reforzar el papel de los profesores regular la función docente nosotros creemos que es preciso cambiar el sistema de acceso del profesorado a la función docente diseñando una verdadera carrera profesional estamos convencidos de que

sus funciones también su autoridad en los centros y defender también a las familias no se puede hablar de educación sin pensar que las familias quieren que se respete su derecho a elegir la libertad de elección su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos y el centro

que se eduquen sus hijos esa libertad que en nuestra opinión garantiza de verdad la calidad porque es

esa mejora de la calidad en su formación igualdad de oportunidades una formación de más calidad que efectivamente

mayores oportunidades para las nuevas exigencias aquí se han apuntado el inglés las nuevas tecnologías oiga es que tenemos que ofrecer

y desde luego sí que desde el partido popular creemos en un sistema educativo exigente pero un sistema educativo exigente también inclusivo e integrador que no deje a nadie por el camino y que efectivamente

a quien más lo necesita pero necesitamos desde luego hacer una apuesta que no ponga vetos a las opiniones de los que tenemos en frente oiga tenemos que construir si queremos hablar de consenso y de pacto lo tendremos que hacer entre todos y lo tendremos que hacer sobre la base de algo no sobre la base del incumplimiento de la ley

en democracia y a partir del segundo turno señorías hablaremos también de las evaluaciones y del miedo que hay aquí en euskadi a que nos evalúen eskerrik asko oyarzabal jauna

gracias señora presidenta señor maneiro en casi todas las cosas que usted ha mencionado

excepto en una en que la educación sea competencia del estado de la administración general del estado en eso no estamos de acuerdo en todo lo demás en la autonomía etcétera pero concédame que nuestra propuesta de hoy trae no solo lo que no queremos sino lo que queremos queremos

que nos permita avanzar que sitúe como usted también acuerda

avanzar en criterios de inclusividad de calidad inclusividad que también tiene que incluir las altas capacidades y la atención a las altas capacidades

sinceramente no sé cómo

yo comprendo que usted tenga obviamente la tarea

de qué evaluación diagnóstica surge heziberri de qué evaluación diagnóstica dónde estaba la necesidad de dónde surge

cuando la tensión era importante positiva para el sistema de dónde surge

cuáles son las mejoras que plantea heziberri para la educación vasca la metodología

cuando estaban los centros educativos empezando a trabajar las ocho competencias que se trabajan no solo a nivel europeo sino a nivel internacional y son las ocho competencias de este siglo doce o catorce competencias diferentes de la universidad de lovaina no explorados en ningún sitio bueno la confederación de ikastolas y qué avanza en la formación del profesorado avanza

un palo soberano a la formación del profesorado en las lenguas

la ampliación a seis años del marco de concierto educativo quizá

en todo se retrocede en todo se retrocede en el plurilingüismo pues no lo veo

ahí en la aplicación de las evaluaciones sí entonces

pues en fin es un fantasma que viene de no sabemos pero desde luego una necesidad por esta comunidad educativa no es no es señor oyarzabal la verdad es que francamente qué le voy a decir es que me parece hasta tierno lo que dice usted mire usted señor oyarzabal qué insumisión me va a decir usted

por invasión de competencias cuando incluso invade las competencias de autoorganización que puede tener esta comunidad eso es insumisión a la ley eso no es una medida activa acaso

señor oyarzabal eso me lo dice usted a mí pero no se lo dice al partido nacionalista vasco

es esa es decir oiga plantear el ejercicio activo

y con todos los recursos a la disposición de una comunidad de una administración educativa

pues en fin entonces esta sokatira con la que conjugamos los diferentes poderes legítimamente dentro de un estado ya me dirá usted cómo queda

a un diecinueve es que esto señor oyarzabal con todos los respetos no es así y usted lo sabe lo que verdaderamente ha llevado al veintisiete coma siete por ciento

el mercado porque claro el mercado cuando había trabajo

en cuanto podían trabajar y ahora no hay mercado es decir ahora tienen que estar los alumnos en el centro educativo porque si no están en la calle y ese es el problema y ustedes desde la lomce

hacen una mera adaptación a la loe no no cambian completamente la filosofía

y eso se ve claramente y eso es lo que recorre

señoría y además he de decirle que no en vano no en vano con las

estaba toda la comunidad con las suyas tanto la ley castillo como esta

y por último por último ya que tengo el rojo por último he decirle señor oyarzabal que la propuesta

fue tirada a la papelera por cospedal cuando sospechó que realmente ustedes ganaban las elecciones pero mire no le arriendo la ganancia porque ni ustedes mismos

no solo por eso sino porque yo conozco a muchos referentes de ustedes en unas comunidades autónomas representadas por ustedes que no quieren la lomce y esa es la mayor prueba

sí gracias presidenta muy brevemente para aclarar que finalmente me voy a abstener ante la transaccional que han firmado eh bildu y el grupo socialista porque no quiero que haya ninguna
duda en relación a la posición política de upyd en relación a la

y sin embargo estamos a favor de muchos de los argumentos planteados por la señora celaá y estamos a favor también de algunos de los asuntos que se plantean en esta transaccional

partidos estamos de acuerdo con que se sitúe a la escuela pública como referente del sistema

de heziberri y la suspensión inmediata de su sistema de evaluaciones y estamos de acuerdo en que hay que avanzar en el cumplimiento de determinados objetivos en términos de equidad

pesamos que las leyes tiene que cumplirse también las que nos parecen malas o injustas y en ese sentido

cumplirla bueno por lo tanto y en conclusión puesto que hay asuntos que nosotros compartimos y otros que rechazamos finalmente vamos a

de sus argumentos por lo que le he entendido a ella en lo que ellos no comparten con upyd fundamentalmente es el que la educación sea competencia del estado

unos cuantos minutos he explicado por qué defiende esto upyd y lo cierto es que no he escuchado a ningún otro grupo político presentar argumentos para oponerse

que nosotros consideramos indispensable que la educación sea competencia del estado también tenemos claro que no hay ningún partido político que a día de hoy defienda esta
idea pero pensamos sinceramente que sería lo mejor para el conjunto de los ciudadanos españoles nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko legebiltzarburua bueno pues seguimos a vueltas

la prueba de tercero está prevista en el propio decreto ese mismo decreto que tuvieron en sus manos antes de ser aprobado ese decreto al que ustedes pudieron hacer aportaciones

ni de la prueba de tercero eso es lo que son ustedes muchas palabras y muchos aspavientos pero hechos más bien pocos

parte hartze prozesurik martxan señora celaá dígame un solo proyecto puesto en marcha en su mandato en el que hubiera mayor participación de agentes educativos sociales y políticos

equivocada sobre esa ha construido un discurso que le convenía aunque no tuviera nada que ver con la realidad y no me ha explicado

de principio a fin y que el gobierno español haga un requerimiento al gobierno vasco para que se modifiquen

usted cuando pueda me lo explica a ver esto cómo puede ser y eso que

mayor grado de responsabilidad a la hora de abordar esta cuestión y este debate por los cargos que usted ha ocupado con anterioridad

usted está tratando de minar al gobierno vasco pero no se esfuerce usted porque no lo va a conseguir

decir es escuchar lo que dice y leer el país de hoy fíjese la alternativa de las regiones del psoe como cataluña otras comunidades rechazan la prueba de la lomce país vasco y canarias señala que no la harán navarra que aplicará su propio examen cantabria extremadura castilla la mancha y aragón que amenazaron con no hacerlo han cerrado un pacto con el resto de las regiones del psoe las citadas

harán la prueba o sea que si lo hace el psoe le parece fenomenal ahora

y la señora celaá también se va a atornillar a la lomce mire usted por dónde

una cosa y hacer otra no es nada nuevo en ustedes también ustedes tuvieron la oportunidad de votar a favor

que solicitaba reservar para euskadi la competencia

no ustedes sabrán mientras tanto en qué se están

nos parece lamentable que no seamos capaces de lograr un mínimo acuerdo uste dugu bide polita dugula aurretik aukeraz betetako bidea dugula aurretik

oiga pero si usted ha venido aquí a reprochar al pnv que cumpla la ley si ha venido aquí a reprochar al gobierno

en pleno y en comisión que usted se opone a que se realicen las pruebas que prevé la ley oiga que están empeñados en hablar de la de tercero de primaria oiga que la que toca hacer ahora antes de junio es la de sexto de primaria con doce años sin consecuencias académicas sin valor

pero con la necesidad de que sea una evaluación diagnóstica que nos permita saber dónde estamos y qué tenemos que mejorar y sobre esa prueba la de sexto de primaria ustedes están pidiendo que no se haga que se incumpla la ley y toca hacerla y el gobierno vasco tiene que hacerla y está tratando

firma hoy una transacción con los que desde el minuto uno desde su propuesta lo que plantean es un boicot a la ley un boicot y la insumisión a la ley usted al final ha firmado con quien plantea un boicot a la ley que plantea un boicot a la lomce

a su ley a esa ley que no sé exactamente con quién la quiere construir usted porque usted dice que

le quedan pocos días pero oiga primero ustedes tienen que ganar las elecciones primero ustedes tienen que ganar las elecciones y luego articular una mayoría que plantee una alternativa a la lomce

que el estado no tenga ninguna competencia en materia educativa y hay otros que quieren que las tenga todas

su planteamiento es que las pocas que tiene el estado no las ejerza

las pocas que la constitución le reserva al estado se ejerzan y la lomce es la primera ley en estos treinta años

sin invadir las de nadie ejercer las suyas las del estado las que plantea la ordenación del sistema las que plantean puesto que el estado es el que homologa los títulos la evaluación

y un título de bachillerato que le va a servir a usted para moverse

alguien le tendrá que decir cuáles son los niveles que usted tiene que alcanzar cuáles son los temarios y cuáles son los contenidos o aquí cada uno va a hacer lo que le da la gana y repartimos los títulos

simplemente se trata de ejercer las competencias y habrá que ver exactamente

buscan y cómo se practica porque nosotros lo que le decía es que estamos abiertos a un pacto por la educación pero un pacto por la educación pasa por que ustedes se bajen ya del burro y dejen ya los discursos de los vetos que ya estamos yo creo hasta el gorro todos los ciudadanos

de la educación tenemos que hablar todos entre todos y sobre la base de lo que hay y no solo con aquellos que su única obsesión es incumplir la ley y poner patas arriba la educación

de manera velada están desarrollando una ley para ver de qué manera la incumplen con mucho postureo

pero lo que dejan es a ver si las asociaciones de padres y los centros la incumplen al final será responsabilidad de los centros si se incumple la ley o no yo creo que es una falta

y del partido socialista yo creo que aquí hay miedo a que nos evalúen

y ustedes nos tendrán que explicar por qué se oponen a que haya una evaluación a los doce años y por qué se oponen a que haya una evaluación a los dieciséis años o a los dieciocho

elegir si quiere ir por una línea más técnica humanista o las ciencias con dieciséis años ya se puede elegir el gobierno

que elijan entre si quieren ir por las ciencias o por

cómo vamos a evaluar a un chico de dieciséis años o de dieciocho qué horror pero cómo le vamos a someter a una prueba de evaluación

qué horror estos planteamientos locos del partido popular evaluar por qué no quieren que se evalúe nuestro sistema educativo por qué no quieren pruebas nacionales de evaluación por qué no vaya a ser señor maneiro que no se estén dando aquí los contenidos

si nos van a evaluar de determinados temarios y contenidos que aquí los alumnos vascos no están dando

es que no no que no se diga que sean secretos los resultados no vaya a ser que aquí haya una carrera de centros a ver

no no secreto cualquier prueba tiene que ser secreta para qué vamos a conocer qué es lo que está fallando oiga cómo van a mejorar ustedes el sistema si no quieren exactamente conocer lo que está pasando si ustedes no se atreven a hacer un planteamiento serio

de lo que son hoy las pruebas de diagnóstico las pruebas al final de las etapas no me vengan con monsergas de los nueve años estamos haciendo aquí un planteamiento serio

simplemente sustituir la selectividad que hoy no sirve para nada

y por eso hay un planteamiento de acuerdo con los rectores señora celaá porque queremos pruebas que sirvan para algo no pruebas que no sirven para nada eskerrik asko desde luego para mantener pruebas que no sirven para nada suprímanla